tres la otan militariza el planeta fomenta la industria de guerra

esa otan belicista militarista imperialista intervencionista busca continuamente medirse con otros gobiernos con otras

con otros organismos a su vez belicistas militaristas imperialistas intervencionistas ya sean estos rusia sea china sea en áfrica sea en oriente esa otan provoca una progresión siempre en ascenso de más recursos para la guerra precisa de material militar

necesitado de ser modernizado de proveerse en más cantidad y con más capacidad destructiva la otan multiplica el gasto gasto ilegítimo que estaría mejor empleado en absolutamente cualquier causa solo con un diecisiete por ciento del gasto que los gobiernos occidentales dilapidan en la otan se podría erradicar la pobreza

que en vez de evitar el riesgo de guerra lo acrecienta cuatro la otan incrementa el uso de armas nucleares y el peligro de guerra

nuclear en suelo europeo la doctrina sobre su uso es clara en caso de peligro seamos los primeros en emplearlo la amenaza

de aquella decisión de instalar escudos antimisiles en las fronteras con rusia

ahora se ha pasado más actualmente a alojar sistemas similares en otras bases como es el caso de la base de rota en cádiz hay poderosos indicios

del empleo de puertos del estado español en el transporte y almacenamiento de armas nucleares cinco europa

de los estados unidos la otan es el mecanismo para someter

a tutela la política exterior europea que no puede decidir libremente cuál es el papel mundial que debe o que quiere

supeditada a la otan europa no puede desempeñar con los objetivos señalados en la carta de las naciones unidas

pero también el de contribuir a las relaciones de amistad entre naciones con respeto al principio de igualdad de derechos

el flagelo de la guerra españa ha mostrado su interés por tener un asiento

belicoso participar en esa escalada de violencia promovida por la otan sin embargo solo ha conseguido mostrar su más absoluta subordinación

a la política imperialista que se diseña en washington seis

osoa badu inposizio hura ere ez dugu ahaztu este pueblo rechazó repudió a la otan

se mantiene encadenado a sus designios a sus intereses o a sus caprichos este pueblo se mantiene encadenado a decisiones que adoptaron otros y de las que no podemos salir es a esto a lo que hoy queremos dar respuesta es a esto a lo que queremos dar una

positiva a aquella decisión que se adoptó en euskal herria en contra de la otan euskal herriaren erabakia errespetatzeko ordua delako gerrarik ez

gracias señora presidenta señorías lehendakari consejero buenos días

breve lógicamente mi grupo votará en contra de la proposición no de ley que nos presenta

estamos a favor de la presencia de nuestro país en estructuras internacionales que nos fortalecen

a nuestros aliados y en ese sentido estamos plenamente de acuerdo con la pertenencia

atlántica como país efectivamente la otan es una

organización militar pero desde luego es mucho más que eso

de sus socios que son democracias occidentales socios que han ido aumentando desde su fundación en mil novecientos cuarenta y nueve ya son veintiocho países pero son muchos más países los que están asociados los que proponen

la verdad es que yo en estos años no he visto y no hemos visto a la sociedad vasca pedir que nos salgamos de ninguna estructura europea o internacional

de los riesgos menos después de las amenazas que observamos en nuestro entorno que observamos en el mundo y que también nos atañen a nosotros a este país

además la unión europea es una estructura política

y la inmensa mayoría de sus países forman parte de la otan para eso para garantizar la paz y desde luego si toca para defendernos

de ustedes es salirnos salirnos de las estructuras

salirnos siempre de los entornos enel que compartimos con otros socios actuación salirnos de españa salirnos de europa salirnos de la otan pues esa no nos van a convencer desde luego no nos

que tienen que convencernos porque sería un error no sería algo no útil para este país este país se beneficia además de la pertenencia a esas estructuras lo que sería salirnos de las mismas y además como siempre el aderezo inevitable el antiamericanismo rampante ese otro aderezo argumental constante no en relación con los debates de estas características

léase en forma de tratados entre la unión europea y los estados unidos toda esa colección retahíla de argumentos siempre

el hecho de ser aliados de una potencia como es estados unidos es una garantía clara importante es una garantía a los efectos de nuestra defensa es una garantía a los efectos de nuestro desarrollo el hecho de pertenecer a estructuras tan importantes como

donde forman parte estados como estados unidos o canadá

bueno la decisión de la pertenencia a la otan la tomaron el conjunto de los españoles el doce de marzo de mil novecientos ochenta y seis que correspondía a quienes formábamos parte de ese estado esa decisión

de ese estado correspondía esa decisión y así lo decidimos algunos sí que pudimos votar la mayoría

queremos una otan más moderna más estratégica en el siglo veintiuno

como dicen muchas de las reflexiones que se abordan en la actualidad e incluso una nueva comunidad atlántica isiltasuna mesedez

la que ha respondido a nuestras necesidades de seguridad ahora bien el fortalecimiento y renovación de la otan sigue siendo absolutamente imprescindible ya no bastan para hacer frente

tenemos que analizar con detalle y realismo el mapa económico y político del mundo y diseñar

acorde con nuestros intereses y objetivos un verdadero plan de acción para el siglo veintiuno también debemos de ampliar nuestro enfoque al definir lo que es el atlántico y ese marco es en el que podemos pensar que hay que definir una nueva estrategia y por eso decíamos que queríamos una otan

atlántico que ya muchas reflexiones

que interesa al país vasco seguir formando parte con españa con europa

para la defensa y también para el desarrollo económico la otan también da oportunidades a nuestras empresas es un marco de relaciones tecnológicas logísticas y científicas en el que también

en definitiva desde el grupo popular somos partidarios de pertenecer a la otan también somos partidarios de una otan más moderna más estratégica y desde luego también somos partidarios de reforzar el papel de españa

ez ituna eta ez varsoviakoa no fue pacto ni de varsovia fue una imposición

a los países que estaban bajo la tutela de la unión soviética un pacto se discute se negocia y tengo muchas dudas de que los países que firmaron o ratificaron el pacto de varsovia negociaron negociaron nada con nikita kruschev usted dice que la otan es militarista

no es de extrañar y me parece que es bastante de cajón es como si le digo que un pacifista es antiviolento pues sí

de la otan puede ser militarista pero sin ejército después añade que la otan es antidemocrática

es que cuando hungría en mil novecientos cincuenta y seis y dos años más tarde checoslovaquia en mil novecientos sesenta y ocho intentaron salir del pacto de varsovia para hacer su camino pues los tanques soviéticos

se encargaron muy rápidamente de convencerles de que estaban equivocados de que era mucho mejor quedarse todos juntos en la casa de rusia

tan pronto cayó el muro de berlín y se afianzó y se fortaleció

los antiguos países del telón de acero eligieron otro camino

porque fue el nombre que gennadi gerásimov el portavoz del ministerio de exteriores de la antigua unión soviética acuñó en una entrevista con la televisión americana él dijo nosotros tenemos hoy la doctrina de frank sinatra

hoy en día dejaremos a los países de la órbita soviética elegir su camino y decidir el modelo

según sus palabras estos países del antiguo pacto de varsovia tan pronto pudieron decidir

noventa y nueve hungría polonia y la república checa dejan el pacto y se pasan a la otan

pasan a la otan y el uno de abril del año dos mil nueve

pasan a la otan y si todos estos países corrieron a pedir protección a la otan es porque tenían pánico a ese democrático pacto de varsovia y a ese mal llamado pacto de varsovia tenían miedo por la experiencia de los tanques de kruschev de los tanques de brezhnev

apuesta por una europa fuerte que tenga su política exterior de seguridad común el tratado de lisboa de dos mil nueve fortaleció

proclama un modelo propio un modelo que apuesta por mantener la

que eso suele evitar bastantes conflictos pero también desarrollar la democracia consolidar el estado de derecho y el respeto de las libertades fundamentales y de los derechos humanos horregatik guk aurkeztu dugu osoko zuzenketa bat

también no eso me parece obvio nazioarteko segurtasuna finkatu

mantener la paz consolidar la democracia el respeto a los derechos humanos

fuerte y dinámica en europa hubiera impedido dictaduras

hubiera impedido masacres como las que se viven hoy en día en siria y en otros países

hubiera impedido millónes de refugiados que tocan a nuestras puertas pero seguramente

espectáculo de la respuesta europea de las instituciones europeas pero sobre todo de los estados miembros que están rechazando

de la otan ni a tratar de convencer a nadie sobre las bondades de pertenecer a la otan creo que es un asunto que excede de nuestras competencias para que este debate no sea por lo tanto una pérdida de tiempo me centrare en lo que creo que es lo más importante

iniciativa evidencia que eh bildu no comprende los procedimientos democráticos el sistema democrático ni la propia democracia creo que fíjense ustedes presentando una iniciativa en relación a la otan eh bildu en esta iniciativa ha puesto de manifiesto esto que acabo de decir que efectivamente no entiende cuáles son los procedimientos democráticos en una simple iniciativa relativa a la otan

en primer lugar euskal herria no decidió nada no era asunto

quien decidía si se pertenecía o no a la otan era el conjunto del país es decir españa y sus ciudadanos los ciudadanos españoles fueron por lo tanto

libremente que había que pertenecer a la otan por lo tanto euskal herria no decidió nada y si alguien dice que euskal herria decidió algo es como en fin querer plantear

cada una de las comunidades autónomas cada una de las ciudades cada uno de los pueblos o cada uno de los barrios de españa y esto es sencillamente inaceptable

cuál es el sistema democrático ni cómo funciona la democracia por lo tanto fue españa la que decidió libremente pertenecer a la otan y por lo tanto euskal herria no decidió absolutamente nada si eh bildu dice que euskal herria dijo queno habría que analizar qué es lo que dijo cada provincia vasca qué es lo que dijo cada ciudad vasca qué es lo que dijo cada pueblo e incluso habría que analizar qué es lo que dijo

amara y habría que ver exactamente en amara qué se votó y qué se decidió y no solamente en amara sino en cada una de las calles de amara y todos aquellos ciudadanos unidos conjuntamente que quizás hubieran dicho que no según el planteamiento de euskal herria bildu tendrían la capacidad suficiente como para

entiende cuál es el sistema democrático y cómo funciona las democracias se podría hacer incluso el planteamiento de

agrupar en un solo conjunto a todos aquellos ciudadanos españoles que dijeron que no a la otan para decir que efectivamente en un cien por ciento votó que no efectivamente esto es fue españa la que libremente decidió pertenecer a la otan

y segundo asunto eh bildu rechaza la pertenencia de euskal herria a la otan por el carácter militarista y antidemocrático de esta organización esto puede ser entendido creo que de una sola manera como una provocación ustedes están hablando de una organización

militarista belicista y antidemocrática no

a ustedes cuál es su posición en relación a esa organización

militarista y antidemocrática que hemos padecido de primera mano y que se llama eta y que ustedes no han condenado por lo tanto teniendo en cuenta cuál ha sido su relación con eta esa sí organización como digo belicista

que hemos padecido más directamente en euskadi su propuesta solo puede entenderse como puro

no han exigido su disolución no quieren que se clarifiquen los crímenes cometidos

han dado y dan la espalda a las víctimas de eta y con su actitud mantenida durante décadas lo cierto es que hicieron posible que siguiera viva provocando centenares de muertos eta señor arzuaga ha asesinado mujeres y niños cargos públicos trabajadores jubilados policías

profesores amas de casa personas que pasaban por allí ciudadanos anónimos y ustedes lo apoyaron o callaron esa sí que fue y es una organización militarista belicista

y ante esa organización ustedes no dicen absolutamente nada sí

durante años que ustedes la apoyaban y a día de hoy siguen sin condenarla y por lo tanto esto es puro cinismo político por lo tanto de esta iniciativa que excede

y argumentar estos dos asuntos que acabo de exponer y alguno pensará y dirá pero gorka siempre les dices lo mismo les recuerdas sus vergüenzas pones en evidencia sus mentiras

sus incoherencias demuestras su cinismo político y se me preguntará quizás

en esos argumentos por qué pretendes cambiar a los que se niegan a cambiar

gracias presidenta eh bildu plantea un debate

donde el debate democrático sobre mayorías y minorías se transforma

cada grupo es muy libre de traer a esta cámara los asuntos que considere convenientes

como la moción que ha traído hoy como consecuencia de la misma para sacudirme esa sorpresa

a comprobar si el asunto figuraba entre los problemas que preocupaban a la ciudadanía vasca pero no entre los veintitrés epígrafes de preocupaciones de la ciudadanía

de modo que hay que concluir que si bildu quiere hacer un recordatorio del trigésimo aniversario del referéndum sobre la integración de españa en la organización del tratado del atlántico norte

y cuál fue su resultado está bien en el ámbito académico y social pero sirve para poco más

el relato que presentan es extraordinariamente parcial hace treinta años fueron muchos los ciudadanos que expresaron su rechazo en euskadi a permanecer en una organización militar que participaba en conflictos militares en el mundo euskadi era una sociedad movilizada en contra del militarismo que había estado a la cabeza de la objeción de conciencia pacífica al servicio militar obligatorio un rechazo pacífico al que quiso dar la vuelta la izquierda abertzale bajo el lema la mili

tres décadas después no existe ni servicio militar obligatorio nadie en la cámara defiende que la mili siga con los terroristas y la otan ha variado su forma de actuar y se coordina con otros organismos internacionales para garantizar la seguridad de todos también

este debate es ya historia fue un episodio que afectó muy directamente a mi partido que creó fuertes controversias y divisiones internas en los socialistas pero es ya historia y tengo mis dudas de que

más bien no tengo ninguna no es competencia de este parlamento sino que este debate se tendría que presentar en el congreso de los diputados

en dicha consulta efectuada no se olvide a nivel nacional goza de plena actualidad como afirma usted en su moción y dónde está escrito que

a anular la permanencia en la otan no ya en euskadi sino también en navarra y la parte vasca de francia

no son capaces de ver lo absurdo de su petición en el título preliminar de la constitución se recogen los derechos fundamentales entre ellos el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo español lo que significa que todos compartimos la capacidad para tomar aquellas decisiones que afectan a la totalidad

o parlamento de una comunidad autónoma le asiste el derecho a tomar decisiones que afectan al derecho de todos

y la ley orgánica de dieciocho de enero de mil novecientos ochenta que desarrolló

en el ámbito que corresponde a la consulta el referéndum sobre la otan tuvo un ámbito nacional no de comunidad autónoma y salió sí por el cincuenta y dos coma cinco por ciento es claro por lo tanto

euskal herria sur o como quieran llamarlo no era el ámbito de la convocatoria el sujeto de derecho de este referéndum fue la ciudadanía española por lo tanto

la ciudadanía vasca no fue el sujeto de derecho del mismo

en el referéndum sobre el estatuto de autonomía que por cierto fue aprobado por el noventa por ciento de los votos emitidos seamos serios los socialistas creíamos que cuando bildu anunció que hacía autocrítica a los resultados de las últimas elecciones

política apartándose de las cuestiones identitarias se referían a otra cosa sin embargo ya estamos viendo que no es así y lo sentimos no compartimos el antimilitarismo selectivo que ha practicado en este país la izquierda abertzale este sentimiento que le llevaba a rechazar

pero que no le impedía jalear a la organización militar de casa y porque todavía está en los papeles

que los mayores de herri batasuna utilizaron para oponerse

que por esa autovía podrían entrar los tanques de la otan se supone que para sofocar la insurrección de euskadi

los tiempos cambian y las sociedades evolucionan ustedes sin embargo están atrapados en el pasado

han cambiado y se han diversificado fue la otan por ejemplo la que impidió en mil novecientos noventa y nueve

de lucha contra la piratería protegiendo entre otros a los atuneros vascos que faenaban en las mismas con el secuestro del alakrana y la piratería somalí hace seis años

por parte de este parlamento la presencia militarista y militar en los barcos de pescadores vascos los socialistas advertimos

internacional y así se forjó la operación atalanta de forma conjunta entre la onu la unión europea y la otan los hechos demuestran que fue

que es la puerta de europa esa era la finalidad de las maniobras conjuntas que realizaron el pasado otoño y al que usted de referir donde vieron efectivos militares de treinta países de la alianza y que tanto le molestan porque algunos puerto de bilbao para llevarlos luego a zaragoza

y a los socialistas nos gustaría que se orientaran todavía más

y de interposición bajo el mando de la onu así como intervenciones de carácter humanitario por ejemplo en la crisis de los refugiados

puestos a echar la vista atrás podemos recordar también en aquella época la adhesión plena de españa a la unión europea pero también

de ellos doce y cinco asesinados solo en dos atentados en madrid diecisiete víctimas mortales

a veces es muy oportuno recordar el pasado el estado social y democrático de derecho en el que españa se constituye garantiza que la ley impera para todos

iguala todos en derechos y en uso de libertades limita los poderes y dificulta abusos

como muchas lecciones de la historia europea nos enseñan quienes se quieren proclamar

acaban comportándose de forma despótica le decía antes señor arzuaga que nos había sorprendido con su iniciativa pues bien

ni mi grupo parlamentario le vamos a sorprender cuando nosotros no votemos a favor de su moción vamos a votar por supuesto en contra de la misma

armas modernas en lugar de combatir al estado islámico el mundo ocho de octubre de dos mil quince la superioridad militar de rusia asombra a los generales de la otan rt canal ruso de noticias cuatro de enero de dos mil dieciséis ayer mismo la guerra más cerca de lo que se cree en este

parecen amenazas y riesgos actuales en la interpelación que hice

constatar con ocasión de la invasión de irak o en los recientes atentados en parís malí o afganistán recientes atentados que a mí me suenan realmente bastante

tal vez para ustedes tenga más autoridad moral que para mí pero el papa francisco plantea que quizás se puede hablar en la actualidad en la actualidad de una tercera guerra mundial combatida por partes

rápidamente por hacer algunas otras menciones el señor maneiro parece que

y parece que le vamos a prestar la misma atención que le presta a la sociedad vasca en este sentido en cuanto

nos hace un discurso atlantista nos hace una apología de la otan y nos dice que está embarcada en la lucha contra el terror pero también parece que está en una pugna

estados que son soberanos como son rusia y china y del cual

riesgos evidentes habla de aliados estados unidos pero también turquía pero también hungría con las responsabilidades que tiene en la crisis de los refugiados

actual en cuanto al psoe ese psoe que dijo a la otan

que era un partido flexible por tener estas posiciones bueno parece ser que les ha sorprendido mucho esta iniciativa

no vaya a ser que se verifique su responsabilidad en que el estado español entre

gracias presidenta sí efectivamente yo he querido utilizar mi turno

mi posición la posición de mi grupo en relación con la

a la otan es importante pertenecer a la otan es garantía de seguridad

y además une a las democracias occidentales ya es un factor democrático y además dentro de su funcionamiento es democrática porque los acuerdos son fruto habitualmente de la unanimidad pero cuando no de reflexiones y de decisiones mayoritarias por gobiernos democráticos así que la esencia de la otan es una esencia democrática es una esencia de defensa es una esencia de seguridad

esos países y esos estados que la forman y también para otros que se ven afectados por su capacidad de actuación también he dicho que

mucho más reforzado

sobre el tema en los países y en las instituciones y en la propia otan y desde luego que sí claro que sí tiene que tener un país en relación

y con otras potencias mundiales pues decidida y lo tendrá y efectivamente hasta cumbres se esbozan sobre el tema pero señor arzuaga de

o de antimilitarismo lo que usted diga y nada es lo mismo o peor lo que diga usted es un sarcasmo y un cinismo

ya sé que su militarismo no es compatible desde luego con la articulación de medidas y estructuras de defensa de las democracias

occidentales sus militarismos son otros son tres uno viejo el del antiguo pacto de varsovia

que se les cayó en la cabeza políticamente hablando cuando se cayó y se derrumbó el muro de berlín uno rancio que tiene que ver más con las dictaduras caribeñas y bolivarianas

etcétera y desde luego otro militarismo dramático del que usted ideológicamente no se ha desvinculado

ese militarismo que usted no condena del o te callas

contra esta sociedad y esa expresión falsamente militar desde luego sencillamente terrorista a usted le ha gustado más por supuesto

internacional de defensa de países democráticos muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aguirre jauna zurea da hitza

eta negoziaketa da ese es nuestro modelo

en el uso de la violencia para arreglar cualquier conflicto político no soluciona nada

no huya ni rehúya el debate si usted plantea una iniciativa asuma qué es exactamente lo que está usted planteando y tenga la valentía de contraponer sus argumentos a los argumentos del resto de grupos en lugar de decir en fin en relación a estos temas prefiero no entrar

vamos a ver no nos haga perder el tiempo en relación a este asunto yo en relaciona a este asunto no he explicado cuál es la posición política de upyd he explicado cómo funcionan las democracias

en qué consiste el derecho a decidir y yo le he dicho y le vuelvo a decir que en aquella ocasión euskal herria no decidió absolutamente nada porque fue el país en su conjunto es decir españa quien dijo que sí a la otan y por lo tanto ese hecho no se puede fraccionar en diferentes comunidades autónomas en diferentes

eso es una mentira eso no entender en qué consiste la democracia y ante esto lo que ha hecho ha sido retirarse a su escaño en lugar de explicar cuáles son sus argumentos no se puede fraccionar no se puede decir que euskal herria dijo que no de la misma forma que no se puede decir qué es exactamente lo que dijo gipuzkoa bizkaia o álava o que dijo san sebastián

vascos esto no tiene ningún sentido la competencia

al conjunto de los ciudadanos españoles a españa y por lo tanto si quiere usted esta iniciativa puede adecuarla y presentarla en el congreso de los diputados pero no aquí

nos ha hecho perder el tiempo únicamente ha servido para que algunos de los grupos le hayamos dicho algunas de estas cosas que yo mismo le he planteado y evidentemente en un primer momento upyd pero finalmente todos los demás grupos han venido a recordarle que aquí

ha sido eta y precisamente han sido ustedes los que acompañaron durante años a eta y precisamente son ustedes los que siguen sin condenar a eta y precisamente son ustedes los que siguen sin exigir la disolución de esa banda terrorista de esa organización militarista belicista

por lo tanto usted nuevamente ha quedado en evidencia usted ha hecho el ridículo político en este caso porque no ha tenido ningún tipo de argumento no ha podido convencer

quedado patente otra vez pues su cinismo político en relación a estas cuestiones en fin por lo menos este debate

para que los diferentes grupos le hayamos vuelto a poner en evidencia

su pasado yle hayamos recordado otra vez su inmenso

ya le he dicho que su moción para mi grupo parlamentario no tiene ningún sentido que este debate ya es historia

dicen que ahora se han producido movimientos ustedes han intentado jalear el treinta aniversario del referéndum

de esta iniciativa en este parlamento y la han presentado exactamente igual

y en los ayuntamientos del país vasco para intentar traer a colación un debate que ya es historia que a nadie de la ciudadanía en el país vasco le interesa en estos momentos

que esa los socialistas podemos ofrecer una explicación sobre para qué ha servido la otan y cómo ha contribuido y debe seguir contribuyendo a la cooperación internacional para garantizar su seguridad la izquierda abertzale aún no puede ofrecer una explicación de para qué sirvió

sobre su apuesta militar ha dicho que una de las razones de que no existiera la otan es el enorme gasto que eso puede suponer en nuestra comunidad autónoma se gastó mucho dinero para proteger a los amenazados por eta

no les escuchamos que aquello era un gasto que se podía haber ahorrado en esta comunidad autónoma muchas empresas decidieron no invertir aquí

autónoma por el riesgo que existía y ustedes no dijeron absolutamente nada ahí no pasaba nada absurdo

nosotros por supuesto que vamos a mantener

nuestra postura vamos a votar que no a la moción presentada por ustedes y vamos a votar en contra también de las otras enmiendas presentadas el señor aguirre ha señalado que

quieren debatir sobre otro modelo yo creo que la iniciativa de hoy la moción de hoy

en esa moción no entra el empezar a debatir un modelo nuevo con lo cual me parece una enmienda

en otro debate diferente refiriéndonos a la otan por tanto votaremos en contra de la misma porque no tiene

y es la postura que nosotros vamos a mantener yo creo que está absolutamente clara y no voy a dedicar también

es muy compleja debe afrontar múltiples aspectos simultáneamente la mejora de los resultados educativos la atención de todo el alumnado incluido el de origen extranjero el acoso escolar los planes

inclusividad e igualdad equipos docentes el mejor aprovechamiento de las tecnologías digitales el paso de un sistema educativo bilingüe

y otros la eficacia del tratamiento de todos estos aspectos

son incorporados a un plan estratégico que marque claramente el camino y permita un procedimiento más globalizado

mejor comprendido por el conjunto de la comunidad todo el sistema educativo vasco es objeto de nuestra preocupación de nuestros cuidados pero la escuela pública por sus características específicas ha de serlo más aún y esto que no es privativo

parece que hoy no es suficiente para el gobierno que no ha querido suscribir esta propuesta pero si leemos fíjense señorías atentamente la respuesta dada por la propia consejera a nuestra preguntas

al desequilibrio entre la red pública y la concertada respecto un ejemplo a la participación del alumnado en experiencias trilingües encontramos lo siguiente palabras textuales dice

resulta necesario subrayar que la red pública y la concertada parten de realidades diferenciadas y sigue se puede afirmar que la situación de partida de los diferentes centros que componen la red educativa vasca en este ámbito

si bien afortunadamente luego concluye que su departamento está trabajando para facilitar el camino y ofrecer las herramientas necesarias para que todo el sistema educativo vasco haciendo especial hincapié en la red pública pueda ir avanzando progresivamente hacia el plurilingüismo

que quiere poner el gobierno y digo quiere porque hasta el momento y a juzgar por los resultados en esta materia lingüística no lo ha logrado once mil alumnos en la pública cursan una materia con el inglés como lengua vehicular

pero partamos precisamente de ese especial hincapié en la red pública por qué especial hincapié en la red pública por qué la respuesta es sencilla la da la propia consejera por sus realidades diferenciadas y por su situación de partida por eso hay que poner especial hincapié

pues señorías para eso es el plan estratégico justamente para eso para permitir que nuestra escuela pública eleve sus expectativas y sea competitiva no desde la perspectiva económica desde la perspectiva del conocimiento como lo es por otra parte la sanidad pública porque la escuela pública

el núcleo central del sistema educativo vasco es el instrumento del que disponen no esta administración todas las administraciones públicas para hacer efectivo el derecho a la educación de todo el alumnado en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia

porque el departamento de educación del gobierno vasco siendo responsable de toda la educación vasca es además titular de la escuela pública es el gestor directo de los centros de titularidad pública

de la gestión del profesorado por eso debe responder directamente de los resultados obtenidos y mejorar impulsar implementar planes de mejora

sin duda alguna es el eje vertebrador del sistema educativo con la ley de la escuela pública vasca que fue fruto de un gran acuerdo de país hace veintitrés años nuestra escuela tomó conciencia de sí misma y empezó a crecer

hemos logrado consolidar con el esfuerzo de todos una escuela pública plural bilingüe democrática al servicio de la sociedad vasca enraizada social y culturalmente en su entrono participativa compensadora de las desigualdades

una escuela además con autonomía pedagógica organizativa y de gestión en la que las familias y el resto de agentes educativos disponen de voz y voto

la escuela pública señorías ha sido capaz de ganarse legítimamente la confianza de la sociedad vasca por su calidad ha hecho la escuela pública con su trabajo a escala

al desarrollo y extensión del euskera hoy es fuerte en innovación y ha de ser cada día más consciente de la necesidad de transitar del bilingüismo

en un mundo globalizado nuestra escuela pública por tanto tiene enormes fortalezas y excelentes profesionales son su fundamento para enfrentar las circunstancias especiales que actualmente condicionan de manera significativa

de algunos centros públicos manteniéndoles en ocasiones en desigualdad de condiciones con el resto y obligándoles a competir a veces con una mano atada a la espalda el alumnado de origen extranjero señorías

pero no hay duda obliga a la escuela pública a hacer esfuerzos adicionales para su tratamiento tenemos una sociedad diversa sabemos que una de las funciones esenciales de la educación es enseñar a nuestros jóvenes a convivir

por eso este aprendizaje que es bueno lo queremos tanto para centros públicos como para centros concertados porque en el tratamiento de esta diversidad

sabemos que precisamos recursos adicionales humanos y materiales para este tratamiento por eso el tratamiento de esta diversidad ha de ser una tarea compartida

también el de las familias de origen extranjero y excluyendo cualquier práctica selectiva

es preciso cumplir rigurosamente todos los preceptos de la ley e incorporar nuevas propuestas sugeridas ya por las familias

y que pueden resultar eficientes a la hora de abordar esta circunstancia la incorporación de agentes sociales y educativos a las comisiones de escolarización es una tarea que podemos estimar pendiente la creación de una oficina única territorial

otro de los elementos que incide en la calidad de los centros es la estabilidad de las plantillas durante la anterior legislatura conseguimos reducir diez puntos de inestabilidad con una oferta pública de tres mil seiscientos plazas este índice ha vuelto a subir

objetivas lo han hecho subir y supera el treinta por ciento de nuestras plantillas un tercer elemento se relaciona con la consolidación de la cultura de la evaluación el manejo en el rigor de los datos

seguimos con la evaluación de cuarto de educación primaria

esos resultados con el plan de mejora de los centros y articular objetivos tangibles de mejora que nos permitan saber

es muy importante tener objetivos tangibles de mejora y además de objetivos generales objetivos específicos para superar las dificultades de los alumnos

su estabilidad su compromiso con el plan de centro y su formación es un asunto crucial como lo es la formación continua de los profesionales un asunto

en esta legislatura quiero referirme también a un aspecto que entiendo gravita negativamente en la marcha contemporánea de la escuela pública

generalizado a la lengua extranjera la escuela pública señorías y voy concluyendo es el instrumento del que dispone la administración educativa para garantizar y hacer efectivo el derecho universal educación de calidad en todo lugar y bajo cualquier circunstancia y es esta naturaleza propia y específica la que le confiere su carácter de centralidad

proponemos que el desarrollo de la escuela pública se articule

en torno a planes estratégicos a un plan estratégico que nos permita ordenar los objetivos coordinar las diferentes actuaciones

y un seguimiento cercano con evaluación rigurosa de los resultados por eso señorías presentamos hoy

para elaborar un plan estratégico antes de que finalice el periodo de sesiones naturalmente un plan estratégico de la escuela pública

mejorar sus expectativas fortalecerla atender sus especiales circunstancias atendiendo precisamente a que la escuela pública tiene que atender atiende a las mayores necesidades educativas del país

por llegar a un acuerdo particularmente el grupo de bildu que conjuntamente con upyd y también el partido popular

hoy en algunos casos no ha sido del todo posible pero seguramente tenemos más posiciones
que nos vinculan que las que nos separan nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá andrea

muchas gracias señora presidenta señorías mi grupo también considera que la mejora de la calidad mejorar la calidad en nuestro sistema educativo salvaguardar la equidad y buscar la excelencia son los retos más importantes de la escuela vasca y de nuestro sistema educativo

años de excesiva autocomplacencia los sucesivos departamentos de educación del gobierno vasco se empeñaban

en relación con los resultados bueno con comunidades autónomas que históricamente iban muy por detrás de la nuestra en la obtención de resultados en la consecución de objetivos

en esas comparativas salíamos siempre bien parados nos comparaban siempre con medias europeas cuando el país vasco es una de las regiones más ricas de la

de nuestra renta per capita de renta per capita similar o de aquellas regiones que gastan como nosotros por alumno sino que

bien parados pero nuestra comunidad yo creo que tiene un recorrido enorme para mejorar en relación a los retos que tiene hoy en día la escuela tenemos

que no tienen otras comunidades españolas nuestro sistema educativo mantiene un equilibrio entre redes la mitad o prácticamente la mitad de las familias vasca matriculan a sus hijas a sus hijos

concertados en ninguna otra comunidad ocurre esto en ninguna otra comunidad española la enseñanza concertada tiene el peso que tiene en la comunidad autónoma vasca por eso

con la proponente con el grupo proponente la preocupación por la escuela pública compartimos la necesidad de poner a su disposición

pero nos parece un error circunscribir ese plan

se refiere a la red concertada entendemos que no podemos en el dos mil dieciséis seguir separando

por redes hay un único sistema educativo y tenemos la obligación del departamento de educación

en su conjunto nosotros por eso creemos que es un error hacer un planteamiento restringido

tenemos la preocupación de que puede haber una brecha cada vez mayor en relación con los resultados centros públicos y centros concertados creemos efectivamente que hay que hablar de inclusión de atención a la diversidad

además buscando que los centros educativos mejoren su calidad salvaguardando la equidad como decía antes pero tratando de buscar la mejora de los resultados al término de cada una de las etapas educativas buscando

y seguramente se nos queda un porcentaje de alumnado

en otras comunidades en los niveles bajos pero estamos también

comunidades son seis siete comunidades las que ya nos superan en resultados cuando están

seguramente necesitamos de otro tipo de instrumentos no solo tenemos que hablar de inversión por alumno porque

no es suficiente sino que tenemos que atender otro tipo de retos de futuro que no solo se arreglan con financiación estamos hablando de

la atención al alumnado inmigrante

el peso que está soportando en relación con esta cuestión la escuela pública es muy importante pero no es posible abordar el problema de la atención a la inmigración y de la inclusión

sin atender a la concertada si queremos que la concertada se comprometa en la

inmigrante hay que trabajar conjuntamente y de la mano con la enseñanza concertada efectivamente tenemos que valorar la necesidad de evitar

y de una manera proactiva a la enseñanza concertada si queremos que todos los centros hagan un esfuerzo

instrumentos de apoyo de refuerzo profesores de apoyo financiación extraordinaria a aquellos centros que se comprometan

restringido a la escuela pública necesitamos un compromiso general de nuestro sistema educativo tiene que ver también como decía la señora celaá

a las nuevas tecnologías con la escuela tres punto cero con la clara necesidad de apostar por el inglés

no no puede afrontar el futuro si no ponemos en marcha de verdad si no hay voluntad política de abordar claramente una

un modelo trilingüe que acerque que reduzca esa brecha que en resultados y hablaremos de eso en el siguiente punto

en materia de lenguas extranjeras no puede ser que nuestra comunidad esté quedando a la cola en conocimiento del inglés

solo por delante de ceuta y melilla en la segunda lengua extranjera

en relación con las lenguas con el inglés necesitamos que claramente este gobierno apueste decididamente por el trilingüismo

es la escuela pública la escuela concertada en el país vasco hace años que se ha venido poniendo las pilas en relación con los modelos trilingües en relación con la apuesta por el inglés

necesitamos motivar también a los profesores es verdad que hay que hablar ayer la consejera participaba estos días está

de la necesidad de reforzar la función directiva necesitamos motivar a los profesores motivar a los profesores porque forman parte porque forman parte nosotros siempre lo hemos dicho son columna vertebral de nuestro sistema educativo necesitamos los docentes sientan de verdad que tienen el aliento del gobierno del departamento con instrumentos claros a la hora de

necesitamos mejorar en definitiva las oportunidades y la capacidad de progreso de los jóvenes vascos en cada uno de los centros pero

con eh bildu porque no creemos que es momento de dividir nuestro sistema educativo entre centros públicos y centros concertados creemos que hay que abordar planes

poner encima de la mesa instrumentos al servicio de todos no solo de una parte de nuestro sistema educativo nos parece que es un error hablar solo de la pública y marginar a la concertada

nos abstendremos aunque efectivamente podamos compartir muchas de las cuestiones que se plantean incluso también a la hora de hacer propuestas concretas en relación con matrícula

los socialistas vascos nos presentaban una iniciativa con la que proponían que

gobierno vasco a la presentación de un plan estratégico en el plazo de dos meses para la consecución de cinco objetivos que ellos consideran fundamentales por un lado posibilitar la mejora de los centros públicos los cuales escolarizan al alumnado

reducir las tasas de concentración del alumnado extranjero en la escuela pública mejorar la estabilidad de los equipos docentes y sus direcciones y reducir los índices de interinidad prestar especial atención al desarrollo y perfeccionamiento de la evaluación de diagnóstico en cuarto de educación primaria y en segundo

esta iniciativa original ha sufrido alguna variación pero en general sus planteamientos y sus propuestas se incorporan

compartir más allá de que nosotros vayamos a mantener nuestra enmienda de totalidad una enmienda de totalidad que lo que propone es

de educación del gobierno vasco a elaborar y presentar antes de la finalización del periodo de sesiones ante la comisión de educación un conjunto de medidas políticas y presupuestarias

materias absolutamente esenciales ellos hablan inicialmente de la presentación de un plan estratégico nosotros lo que

es la elaboración o la puesta en marcha de un conjunto de medidas concretas políticas y presupuestarias que pudieran ser además presentadas

los objetivos que nosotros planteamos en esta enmienda primer objetivo

en los centros educativos en nuestra opinión efectivamente consideramos que la escuela pública debe ser la base del sistema educativo vasco segundo objetivo

en la escuela pública las más recientes estadísticas muestran que sesenta centros en euskadi tienen aulas con más del cincuenta por ciento

extranjeros en vitoria por ejemplo diecinueve colegios solamente uno concertado tienen un porcentaje superior al treinta por ciento y hay casos concretos en el que la cifra crece hasta rebasar el ochenta por ciento mientras la red pública está recibiendo de manera mayoritaria

de origen extranjero la red concertada se está convirtiendo en una especie de refugio para muchas familias autóctonas de clase media y clase la interculturalidad es enormemente positiva podemos compartirlo pero la guetización es enormemente negativa

perjudica a todos pero perjudica especialmente a los alumnos inmigrantes en los últimos tiempos se ha producido un deterioro en los colegios públicos y se fomenta

la separación del alumnado según el color de su piel origen étnico clase social o religión nos parece una base nefasta para intentar conseguir una sociedad más justa

y no de exclusión así concluía el manifiesto hecho público hace pocas semanas en un centro cívico de vitoria

todos los sindicatos y otras organizaciones educativas y sociales este manifiesto

de los centros públicos creo que son reflexiones

tener en cuenta tercer objetivo que nosotros planteamos con esta enmienda estos objetivos la verdad es que la mayoría de ellos están incorporados

señalábamos es mejorar la estabilidad de los equipos docentes y sus direcciones y reducir la interinidad del profesorado los sindicatos han denunciado recientemente

del profesor y esto evidentemente tiene incidencia negativa en la educación en la enseñanza los sindicatos han denunciado que el sistema educativo vasco tiene un déficit

sustancialmente en los últimos años los sindicatos reclamaban reclaman al gobierno que cambie sus políticas educativas un aumento de la inversión

del poder adquisitivo perdido por los trabajadores entre otras medidas consideramos que estos planteamientos estas ideas estas reivindicaciones son medidas justas que nosotros podemos compartir desde dos mil diez la caída del poder adquisitivo de los profesores es de más del trece por ciento

dependiendo del cuerpo el gobierno vasco invierte solo el tres coma seis por ciento del pib en educación frente el cinco por ciento en la unión europea y el cuatro coma tres por ciento que se dedicaba en euskadi hace

de los más de veintitrés mil profesores que operan en el sector

temporal y esto también tiene incidencia negativa en la educación

la temporalidad y la precariedad tienen incidencia directa negativa en la calidad de la enseñanza por lo que procede corregir todas estas medidas injustamente tomadas en los últimos tiempos muchas de ellas como consecuencia o con la escusa de la crisis económica

en ocasiones no se cubren las sustituciones o se cubren con retraso lo que lleva la pérdida de cantidad de horas de curso y al aumento de la carga de trabajo del resto de los docentes del centro además sigue incrementando la edad media del personal docente

de totalidad que mantenemos generalizar

adoptando la normativa y el apoyo económico necesario para ello esto último obviamente garantizando en todo caso algo que hasta el día de hoy

de elección lingüística en lengua materna sobre este asunto

en el siguiente punto en todo caso para la consecución de todos estos objetivos de los objetivos planteados en nuestra enmienda de los objetivos planteados en la enmienda de transacción lo que se necesita es voluntad política y presupuesto y a día de hoy podemos decir y concluir a la vista de los hechos este gobierno esta consejera en concreto no tiene ni voluntad política ni se destina el presupuesto suficiente para llevar a cabo

retos que tiene a día de hoy la educación y en concreto la educación pública vasca espero que de todo este debate

se pueda aprobar algo y a partir de ahí evidentemente se le inste al departamento de educación a tomar una serie de medidas que nosotros consideramos absolutamente fundamentales

eta gizarte zuzen elkartu eta aktibo bat lortzeko asmoz los pilares sobre los que se asienta el plan heziberri dos mil veinte son dos el primero de ellos es el largo y fructífero recorrido realizado por nuestro sistema educativo hasta

y exitosas experiencias educativas que han contribuido a la construcción de una cultura pedagógica

y el segundo de los pilares es la participación de los diferentes agentes la educación ha de ser responsabilidad de todas y de todos y necesita

y de todos para garantizar su mejora su viabilidad y su permanencia en el tiempo

del modelo educativo pedagógico el segundo de ellos los decretos curriculares de la comunidad autónoma del país vasco y el tercero dar pasos hacia una ley vasca de educación una vez establecido el marco educativo pedagógico desde

y antes de ayer como todos fuimos presentes en comisión se presentó

le solicitó al gobierno en noviembre del año dos mil catorce un plan

esta presentación del plan de mejora del gobierno que tuvo lugar hace dos días coincidente también en el tiempo con esta proposición

creemos que cubrirá todas las necesidades descritas y al cual una vez podamos analizarlo con tiempo porque ya se nos comentó por parte de la consejera que hoy mismo se colgaría

podremos plantearle las mejoras que cada uno de los grupos creamos que son planteables o incluso debatibles heziberri es un marco elaborado y mejorado con los agentes que recoge el trabajo que durante todos estos años hemos hecho en común

el plan de mejora que nos presentó el departamento en comisión cuenta con todos

que permiten valorar el camino de nuestro sistema educativo abiertos a mejorarlo como siempre ha estado este departamento pero solicitamos a los grupos

un plan estratégico únicamente para la escuela pública vasca sin antes conocer en profundidad el que nos presentó hace dos días la propia consejera un plan de mejora presentado por el departamento

en noviembre del año dos mil catorce tal y como comentó la propia consejera y la viceconsejera con un poquito de retraso efectivamente pero traído ya a este parlamento

que con el que el departamento ha dado también cumplimiento a la disposición adicional quinta del decreto que regula el currículo de educación básica no obstante también y por hacer alusión a lo que solicita el partido socialista y a la enmienda de transacción a la que han llegado hincapié en muchos aspectos dirigidos exclusivamente o prioritariamente a los centros públicos por ejemplo objetivo tercero de la línea tres está dirigido a los centros públicos ofertar formación inicial y permanente para que los equipos directivos de los centros educativos públicos

dice establecer la carrera profesional del personal docente tomando como referencia el mapa de competencias docentes o toda una línea estratégica exclusiva de los centros públicos como es la línea sexta en la que habla de profundización

para conducir a los centros hacía la excelencia esa excelencia que todos buscamos en el segundo párrafo de la proposición no de ley se pedía tratar de incluir la problemática de la concentración de alumnado extranjero en el escuela pública y podríamos añadir que dentro

que en otros nos pareció muy interesante la reflexión que hizo la consejera el pasado veintinueve de febrero diciendo la necesidad de abordar esta problemática

el ámbito educativo sino también con otros departamentos del gobierno instituciones como los municipios o las propias diputaciones abordando el hecho de la inmigración en todas

como pueden ser los aspectos urbanísticos que al final redundan directamente en que haya

tan elevado de alumnado inmigrante en determinados centros el departamento en esa comparecencia nos dio

por una escolarización y una intervención inclusiva de todo el alumnado de euskadi la adaptación del mapa escolar en el caso de vitoria gasteiz

la obligación de hacer pública en el aplicativo de prematrícula el uso

el consejo escolar puso en marcha en el curso dos mil catorce dos mil quince el programa hamaika esku para priorizar el proyecto

vulnerable y con mayores dificultades en la normativa de admisión el departamento ha advertido sobre las consecuencias

se guarda el diez por ciento de sobrerratio en la matriculación de este próximo curso

y las propias comisiones de escolarización trabajan ya de forma coordinada desde finales del curso pasado bajo la dirección de centros

comisiones de escolarización por lo tanto estamos hablando de medidas nuevas medidas que no habíamos visto que otros gobiernos habían puesto en marcha y que se han establecido por primera vez

están en marcha por lo tanto demos tiempo a que esas medidas puedan dar

a una escolarización inclusiva del alumnado en cuanto a las medidas para mejorar la estabilidad de los equipos docentes y sus direcciones reduciendo el alto grado de interinidad este gobierno ha dado continuidad a las políticas de fomento

ha mantenido todas y cada una de las medidas tanto formativas como de otro tipo y en la última convocatoria se consiguieron noventa proyectos más de direcciones estables también hablaba la proposición no de ley del plan de evaluación e investigación la evaluación ya está planificada en el plan de mejora del sistema educativo vasco esperemos que satisfaga la demanda de lo contrario pues ya tendremos tiempo de volver

y finalmente hablaban también del calendario de generalización integral y progresiva del trilingüismo el calendario de generalización progresiva está en el plan de mejora presentado el pasado

entendemos que concluirá en el año dos mil veinte como el resto de las líneas del plan presentado el otro día en el que todos los centros año en el que

plurilingüe adaptado eso sí a cada una de sus situaciones sociolingüísticas como abordamos en nuestra enmienda debemos darle relevancia a las medidas de formación permanente del profesorado y de las familias

hacia una educación plurilingüe para llegar a la generalización de la primera lengua extranjera como lengua vehicular eta eh bilduren ordezkariari

doblado de esta manera y quieren pasarlo a su posición natural a veces

enderezar va a resultar va a resultar señorías

a petición del plan de mejora de los resultados escolares de todo el sistema educativo la pidieron ustedes y he de decirles que esta cámara acordó

a propuesta socialista y lo acordó y lo pidió y dos años y medio después como se ha reconocido

nos presentó un plan de mejora de los resultados escolares que es susceptible que tiene que

ese plan para ser un plan de mejora pero vamos a ver por esta línea por la línea que ustedes han llevado aquí en sus respectivas intervenciones todas las medidas de discriminación positiva en relación a la mujer en relación con las personas con necesidades educativas especiales en relación a cualquier cosa serían absurdas

que las administraciones públicas y esta no es solo una cuestión que está en toda la legalidad vigente sino también en la constitución han de remover los obstáculos

y grupos avancen en pie de igualdad en igualdad de condiciones sino señorías y señora corrales

qué otro sentido podría tener que la propia consejera contestara me contestara en una pregunta por escrito que

por qué porque parte de una realidad diferenciada con la concertada por qué porque la situación de partida es diferente oiga

es decir señores aquí hay que hacer especial hincapié en la red pública por qué

pues porque sin la red pública que como ustedes bien saben como ustedes bien saben configura el cincuenta por ciento o algo más del sistema educativo vasco sin la red pública sin su mejora sin su elevación de expectativas no podremos alcanzar la excelencia sería imposible

qué escándalo solamente vamos hablar de la red pública pero oiga

si hemos pretendido y justo cuando va a tocar el gong del final de la legislatura es cuando nos dan los resultados cuando se inician

epígrafes cajones vacíos para resultados justo entonces justo entonces pero oiga eso ya estaba pero ahora qué encontramos

encontramos circunstancias diferentes en la escuela pública que nos hacen hacer especial

en que la red pública precisa un plan estratégico eso es minusvalorar y eso es dividir en absoluto en absoluto pero si ustedes tienen una familia y resulta que en una familia

ustedes se volcarán en las circunstancias especiales para qué para elevarlo

como para que efectivamente todo el camino todo el camino que tiene que hacer el sistema educativo vasco en su conjunto sea hacia la excelencia y en pie de igualdad ese es el objetivo

y no otro no otro por favor no empiecen a contarme estas cosas porque es que cada uno de sus discursos cada uno señorías de sus discursos

en que era absolutamente necesario el plan estratégico mire usted ustedes dicen es que ya tenemos el heziberri y es que ustedes no lo han visto no han visto todo lo que pone en el heziberri oiga será culpa nuestra que no hayamos visto todo lo que pone en heziberri lo que pone en heziberri no lo que pone en el plan de mejora de los resultados escolares por cierto que ustedes no lo entregaron ustedes no lo han entregado oiga

con el resto de los sistemas educativos europeos y españoles nos ha desalineado no hay sistema educativo hoy que aporte catorce competencias o trece competencias al sistema educativo por tanto

así que señorías yo creo que con todos sus discursos lo que han venido a hacer es confirmar

que es preciso un plan estratégico para la educación pública que no divida que no separe que esté incardinado

de la mejora de los resultados escolares pero las circunstancias especiales que actualmente tiene la educación pública merecen especial atención y para eso solo para eso y nada más que para eso y no solo es el plan estratégico de la educación pública

la idea principal con lo que nos debemos de quedar todos o nos deberíamos de quedar todos es que

resolver las dificultades de una realidad tan importante en la educación excluyendo una de las partes de ese sistema educativo lo que hoy pretenden los grupos que han firmado la enmienda de transacción es resolver

que existen en la escuela pública vasca dejando al margen a la red concertada parece mentira señora celaá que usted haya sido consejera porque solucionar una dificultad o unas dificultades que requieren la implicación las aportaciones de todas las redes

que es lo más óptimo teniendo la experiencia que usted tiene claro que es difícil claro que es complicado buscar soluciones pero para trabajar este asunto realmente forzosamente es necesaria la implicación de ambas redes porque este gobierno quiere

educativo vasco pero no dejando de lado a nadie no se puede solucionar una parte del sistema dejando de lado vuelvo a repetir

el partido socialista en el año dos mil catorce nos pidió un plan de mejora hacia la excelencia y ahora en cambio en el día de hoy nos pide

para la escuela pública vasca qué ha cambiado desde entonces señora celaá o qué ha cambiado desde que ustedes presentaron

este yo le llamaría esqueleto de plan de mejora de resultados del sistema educativo vasco que aunque tiene fecha de

a conocer su contenido hasta el año dos mil once dos mil doce por insistencia de este grupo parlamentario cuando estábamos en la oposición nosotros un plan

a todo correr un plan que no es sino un montaje y usted dice le dijo el otro día a la señora consejera que no hay objetivos concretos que no hay medidas concretas

plan de mejora un plan de diecinueve hojas qué había señora consejera tanto han cambiado las cosas desde que usted era consejera y está

o en esta misma legislatura usted nos pide un plan de mejora para el sistema educativo vasco y hoy nos pide un plan estratégico para la escuela pública vasca también se lo digo a la señora arrondo están marginado una parte del sistema

no pensaba yo que en este caso eh bildu iba a llegar a un acuerdo apostando por un plan estratégico para la escuela pública vasca dejando de lado excluyendo a la red concertada pero bueno hemos visto que es una realidad y hoy mismo así lo ha hecho

a todo el sistema educativo no se puede hacer política y es lo que hoy en este pleno estamos viendo que

este asunto la educación hay que gestionarla y es lo que este gobierno está haciendo actualmente gestión a través de medidas concretas medidas que van a ir dando

medidas que no puso en marcha anteriores gobiernos ni el de usted señora

con el anterior departamento de educación vuelvo a repetir claro que es complicado es difícil de buscar

a ninguna de las partes del sistema educativo hay que trabajar hay que coordinar
recibir las aportaciones de todos porque no pretendamos solucionar un problema sin tener en cuenta al otro eskerrik asko eskerrik asko corrales andrea

muchas gracias señora presidenta señorías actualmente vivimos en un mundo globalizado por lo que resulta imprescindible y por eso traemos

resulta imprescindible el manejo del inglés

en la mayoría de las áreas del conocimiento y del desarrollo el aprendizaje de distintos idiomas para los estudiantes a nuestro juicio es ya una necesidad primordial

ya que no solo acrecienta las posibilidades laborales sino que enriquece la vida social y cultural de hecho euskadi

es hoy la comunidad en la que mayor demanda de puestos de trabajo exigen el conocimiento del inglés por eso creemos que hay que hacer un esfuerzo

quedarnos atrás y eso es lo que está pasando señorías nuestra comunidad viene volcándose

euskaldunización desde hace treinta y cinco años y llevamos

en el impulso del inglés y de las lenguas extranjeras nuestro sistema educativo con respecto al resto de comunidades es el que más fondos destina por alumno escolarizado lo hemos dicho en varias ocasiones según el informe del consejo escolar del estado somos la comunidad que mayor

por alumno realiza pero ya ha quedado demostrado

de financiación en educación no siempre tiene porqué ir aparejado a la obtención

creemos que es un reflejo de ello con lo que gastamos

en educación deberíamos estar encabezando como decía antes el ranking educativo de los países de la ocde y lamentablemente en relación con los resultados

además en nuestro caso es especialmente alarmante en lo que respecta a ese aprendizaje

donde obtenemos un claro suspenso en relación con el resto de comunidades autónomas españolas no ya comparándonos con las regiones que tienen nuestra renta per cápita en europa sino que comparándonos con otras comunidades autónomas españolas seguimos a la cola

es ya fundamental el aprendizaje y el dominio del inglés especialmente y así aparece reflejado en todos los informes los últimos informes del consejo escolar del estado y del consejo escolar de euskadi

recién aparecido fecha dos mil quince en el caso del consejo escolar del estado los últimos datos se refieren al dos mil trece

los dos revelan que nos estamos quedando atrás en el aprendizaje de lenguas extranjeras en primaria señorías de

la enseñanza del inglés está generalizada en toda españa si nos centramos exclusivamente en los centros públicos

o contenidos en inglés por encima de la comunidad autónoma vasca se encuentran castilla y león madrid aragón castilla la mancha murcia andalucía

solamente cuando añadimos a la red concertada que en eso están por delante de la escuela pública vasca cuando añadimos a los centros concertados vascos

nos colocamos por delante de algunas comunidades el consejo de ministros de la unión europea fijó ya en dos mil nueve que no es antes de ayer fijó ya en dos mil nueve los objetivos estratégicos

con la vista puesta en el horizonte dos mil veinte allí establecía que para ese año para dos mil veinte

deberían estar matriculados en una segunda lengua extranjera el país vasco también ocupa un lugar mediocre entre las autonomías

en una segunda lengua extranjera entre los estudiantes de doce

en secundaria en la actualidad en nuestra comunidad solamente están matriculados el veintidós

del resto de españa y casi el cincuenta y uno por ciento de la media europea las tres comunidades con mayores porcentajes

galicia que cuenta también con lengua propia galicia casi el setenta por ciento de sus alumnos con una segunda lengua extranjera canarias el sesenta y cuatro por ciento asturias el sesenta y dos por ciento señorías

y la comunidad autónoma vasca con un mísero veintidós por ciento a la cola

somos la penúltima de las comunidades autónomas españolas en el aprendizaje de la segunda lengua extranjera son en países con los que muchas veces nos queremos comparar y en los que el departamento de educación se trata de comparar como luxemburgo finlandia italia están ya prácticamente

asignaturas en dos lenguas extranjeras si hablamos de primaria el resultado vuelve a ser

señorías en primaria solo tenemos por detrás a ceuta y a melilla además la unión europea estableció también que para el dos mil veinte la mitad de los jóvenes

deberían manejarse como usuarios independientes en la primera lengua extranjera en inglés alcanzar un nivel equivalente al be uno en inglés en europa están ya en el cuarenta y dos por ciento la ratio de alumnos que alcanza ya un nivel be uno en inglés

el veintisiete por ciento acredita ya un nivel de usuario independiente en inglés y en nuestro caso el consejo escolar de euskadi ni siquiera aporta datos se limita a decir en su informe que esa meta lejana por último señorías la unión europea fijó también criterios en relación con la formación en el extranjero de los alumnos y de las alumnas de las distintas regiones europeas

entre un seis y un diez por ciento de los jóvenes con titulación de fp deberían pasar un tiempo de formación

se han facilitado datos específicos al consejo escolar de euskadi ha reflejado en su informe que la distancia respecto a ese objetivo

como decía en una de las comunidades con mayor demanda de puestos de trabajo

exportadora nuestra empresa es una empresa que ha apostado claramente por la internacionalización y no podemos de hablar de sistema educativo de futuro no podemos hablar de retos

si no hablamos de un sistema educativo trilingüe nuestra escuela se quedará atrás seguirá perdiendo puestos si no

ya son años ya hace ya muchos años que venimos insistiendo que el inglés la apuesta por el inglés el modelo trilingüe

y un reto fundamental de nuestro sistema educativo que tiene que haber voluntad política que tiene que haber instrumentos para que nuestros centros educativos

es es el mayor yo creo que es el mayor reto que tenemos es el mayor favor que podemos hacer hoy a las

regalo que les podemos hacer señora consejera aprovechando que está aquí el lehendakari no está el mayor el mayor la mayor contribución que hoy podemos hacer a las jóvenes generaciones si queremos asegurar su futuro un futuro también

en el conjunto en el marco de la unión europea la mayor contribución es apoyar es apoyar el inglés en la escuela vasca sin el inglés nuestros alumnos nuestras alumnas estarán cojos estarán cojos el día de mañana ese es el principal reto de nuestro sistema educativo tenemos que hablar de calidad tenemos que hablar de integración

pero sin el inglés nuestro sistema educativo estará cojo necesitamos que esa sea la gran apuesta de los próximos años nuestro sistema educativo está ya capacitado para abordar y mantener una línea

posicionamiento claro en relación con la euskaldunización se ha hecho un esfuerzo

nuestro profesorado está euskaldunizado está capacitado para enseñar a los jóvenes vascos en euskera nosotros no tenemos profesores capacitados y con competencias suficientes para extender para generalizar el inglés en nuestro sistema educativo y ese tiene que ser el gran reto

si no nos ponemos las pilas ya llegaremos tarde perderemos el tren llegaremos con retraso

ya es un reto fundamental y un objetivo claro de todos los países de nuestro entorno yo creo que este debería ser un asunto de encuentro

para que todos los centros asuman que es el inglés el gran reto
de futuro nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna

señorías el ochenta por ciento de los niños y niñas del norte de europa hablan inglés en la escuela aquí

señorías la red concertada no precisa

durante esta legislatura del impulso público para convertirse progresivamente en una educación trilingüe

y todas las ikastolas trabajan materias utilizando el inglés como lengua vehicular la red pública sí necesita el impulso porque la titular es la señora consejera es el departamento de educación política lingüística y cultura y sí necesita el impulso

más allá de decir que la meta está lejana efectivamente el consejo escolar de euskadi el consejo escolar de euskadi en su informe dos mil doce dos mil trece

en educación primaria el grupo de la experiencia es decir el que hace

registra su principal progreso un diecinueve por ciento en el nivel a dos mientras que el grupo de control baja a la uno

enseñanza secundaria obligatoria es importante esto señorías porque tenemos que tomar una decisión al respecto el grupo met el grupo marco educación trilingüe

el nivel be dos o be uno en un sesenta y ocho por ciento es verdaderamente espectacular un sesenta y ocho por ciento

en tercero de la enseñanza secundaria obligatoria mientras que quien no lo hace se queda en un dieciséis por ciento en el be uno y en un tres por ciento en el be dos espectacular pero

presentó la señora consejera ella misma reconoce que

los grupos experimentales solo los grupos experimentales superan la puntuación media de euskadi

esto dice hablando de las matemáticas por tanto por tanto señorías que se haga

no solo no perjudica no solo hace mejorar

sino que además mejora ese grupo en matemáticas

en las lenguas cooficiales por tanto cuál es la perdida ninguna cuál es la ganancia

con estos resultados no hay impulso para la escuela pública apenas no hay impulso apenas tenemos

en la red concertada haciendo inglés como lengua vehicular para una materia

en la red pública circunstancias especiales

quien es titular el gobierno el gobierno tiene que hacerlo pero hete aquí que además

comparecencia se presentó y se afirmó que había grupos que se les había puesto más inglés aún inglés plus y que habían sacado mejores resultados que el marco educación trilingüe

oiga cómo no primero más horas mejores resultados pero es que además en ese grupo de inglés plus se ha introducido se ha incorporado

ochenta por ciento educación concertada que además es un grupo que hace extraescolares en inglés y que además es un grupo elegido en el marco educación trilingüe que se propuso tanto como en el uno como en el dos primero eran dirigidos a todos los alumnos no hubo ninguna previsión de vamos a poner a los que más saben y a los más listos y a los de mejor condición social y económica

para conseguir los resultados del plan piloto que hubiera una muestra suficientemente representativa en relación a la capacidad socio económica de los alumnos a su capacidad cognoscitiva

por tanto el único plan experimental científicamente evaluado en esta comunidad es el marco de educación trilingüe

el único el único evaluado científicamente

y que arroja esos resultados y qué queremos con eso señorías

es que habida cuenta de que de nuevo la red concertada lleva su propio impulso las ikastolas llevan su impulso y todas lo están haciendo con las

porque reitero el met era un plan piloto experimental pero que nació con vocación de asentarse

y como plan piloto si no es necesario establecer

eso ha de adaptarse ha de ajustarse precisamente para que pueda seguir avanzando pues bien señorías lo que pedimos en esto lo que pedimos aquí traído por el grupo popular es un plan estratégico

que nos permita de generalización progresiva de la lengua extranjera

que nos permita avanzar en esta materia porque si no avanzamos en esta materia es decir en el conocimiento del inglés no seremos

o alemán bien pero el inglés no solamente es la lengua

la lengua común para europa para la ciencia sino que además es la competencia transversal para un puesto de trabajo

que nuestros alumnos de la educación pública por no poder acceder a estos bienes se vean en desigualdad de condiciones con otros a la hora

o de viajar por el extranjero en un mundo globalizado por eso una vez más

volvemos a reiterar nuestra petición de no perder el tiempo no podemos perder el tiempo en esto

y la distancia es mayor no podemos aceptar brechas lingüísticas ni entre redes ni entre centros educativos de la comunidad

así que señorías avancemos por favor y avancemos por el camino evaluado que nos permite

gracias presidenta muy buena iniciativa del grupo popular

buena justificación y buena intervención también de la señora celaá es difícil mejorar sus intervenciones porque han resumido perfectamente bien ese reto que tenemos como sociedad vasca incluir el aprendizaje del inglés para que las cosas cambien de aquí al futuro creo que muchos de nosotros echamos de menos no haber podido aprender inglés cuando éramos más jóvenes

amigos nuestros compañeros nuestra generación lo echa de menos y a pesar de que unos u otros

este idioma lo cierto es que en fin creo que echando la vista hacia atrás echamos de menos ese aprendizaje tan indispensable del inglés no solamente para trabajar sino para convivir para viajar y para disfrutar en general de la vida por lo tanto

donde hicimos mucho hincapié en la defensa y desarrollo del sistema trilingüe de enseñanza incluyendo el respeto escrupuloso

el inglés y para que los profesores puedan aprender y perfeccionar sus conocimientos de inglés a través de enmiendas

rechazadas por el gobierno vasco o por los grupos que apoyaban o apoyan al gobierno vasco y lo cierto es que esas enmiendas fueron también rechazadas durante la pasada legislatura por aquellos grupos que apoyaban al gobierno tanto el grupo del partido popular como el grupo

por el grupo nacionalistas vascos digo esto porque creo que es momento de recordar que en política como en la vida lo importante son los hechos

enormes oportunidades para incrementar el presupuesto destinado al inglés y el presupuesto destinado a la mejora y al aprendizaje por parte de nuestros profesores en ese sentido quiero recordar que el gobierno socialista apoyado por el grupo popular se convirtió en una oportunidad perdida también en este ámbito oportunidad perdida para priorizar el inglés como corresponde a una sociedad que pretende ser avanzada y para garantizar la libertad de elección lingüística en lengua materna como corresponde a una sociedad que se pretende esté conformada

plenamente vigentes ahí nuestra crítica al pp por lo tanto ya que cuando pudo tener influencia para que se dieran pasos significativos en el modelo trilingüe

es evidente que ciertamente no hicieron o no quisieron influir de forma determinante en el gobierno vasco del señor

se mantuvieron más bien mirando a las musarañas en relación a esta cuestión lo cierto es que

saben más los propios alumnos que han tenido la suerte de aprender inglés por su cuenta que quienes les están dando clases de inglés

como para dar otras asignaturas en ese idioma esa es la realidad del sistema actual está muy bien lo que pide el señor oyarzabal pero habría que empezar por esto por dedicar un esfuerzo presupuestario importantísimo para que un número significativo de profesores

un nivel alto de inglés lo que implicaría evidentemente liberalizaciones y contratar sustitutos que ya sepan inglés en fin lo mismo que se ha hecho con el euskera

millónes de euros anuales con la diferencia siguiente que nadie tiene en cuenta y que les quiero exponer sin que por ello

parlamento cuando un niño o joven aprende euskera el número de personas adicionales con las que puede comunicarse

inglés son millónes este es un hecho evidente que simplifica las razones por las cuales es importantísimo aprender inglés sí cuando un niño o un joven vasco aprende euskera el número de hablantes adicionales con los que puede comunicarse es cero

inglés son millónes salvo en fin los franceses del sur de francia que pudieran conocer el euskera que tampoco son muchos en fin la cuestión es que aquí se sigue dedicando dinero para la euskaldunización

y sin embargo para aprender inglés se hacen muy pocos esfuerzos la prueba es bien clara somos la primera comunidad en resultados escolares donde menos fracaso escolar hay

etcétera y sin embargo obtenemos de los perores resultados en idiomas en primaria la enseñanza del inglés

a todos los escolares pero la diferencia la aportan los centros que imparten varias asignaturas en inglés

en esos resultados la red pública vasca tiene por delante como se ha dicho a castilla y león madrid aragón castilla la mancha murcia andalucía

canarias o navarra en secundaria los resultados son parecidos y tenemos por delante a extremadura castilla la mancha andalucía murcia madrid canarias castilla y león y cantabria un lugar muy mediocre para ser la comunidad autónoma con los mejores resultados escolares globales y donde más dinero se invierte en educación algo falla

la voluntad política si nos vamos a los alumnos que aprenden dos lenguas extranjeras la situación es casi dramática ya que solo tenemos por detrás a ceuta y melilla en primaria y a cataluña en secundaria oficiales del consejo escolar del estado un dato más en euskadi para ser profesor de inglés se exige menos titulación que para dar euskera lo que ratifica lo que decía

la hilaridad de los alumnos que por su cuenta y riesgo aprendieron inglés la situación además es dramática en la escuela pública ya que mientras la red concertada avanza la pública

como dato mientras cincuenta y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve chavales de la privada están integrados en modelos trilingües

en la red pública es decir no representa ni el veinte por ciento del total por eso nos parece interesante lo propuesto por el grupo popular en su punto tres

es decir reformular la normativa de ayudas para la implantación de modelos plurilingües algo que se ha recogido en la transaccional que hemos firmado en fin un enorme fracaso un fiasco del departamento de educación preocupadísimo

global integral de los niños y adolescentes de euskadi ya que sin inglés se les van a cerrar muchísimas posibilidades vitales y muchísimas salidas profesionales

y vivencias de todo tipo por eso es tan importante el inglés por otro lado no tiene ningún sentido que haya niños que vayan a la escuela pública y a la salida de la escuela

y que me parece que evidencia que algo falla en este modelo

únicamente de este departamento de este gobierno esto es responsabilidad

todos los departamentos de educación anteriores y de todos los gobiernos anteriores no haber tenido la suficiente amplitud de miras como para haber tenido en cuenta

inglés en fin a día de hoy creo que está claro que la actual consejera está desnortada

prueba de ello es también este tema de la tercera lengua en definitiva lo que defendemos es más inglés mejor inglés para todos y para todas trilingüismo y evidentemente también por nuestra parte mantenimiento o perfeccionamiento garantía

de elección lingüística lo recogido en nuestra enmienda de

perfectamente razonable que espero en fin pueda ser aprobada en la sesión de hoy de este parlamento nada más y muchas gracias

ados gaude a llevar las medidas necesarias para tratar de alcanzar los objetivos estratégicos de la unión europea en educación y formación de lenguas extranjeras para e laño dos mil veinte izan ere guk honako

pedimos al gobierno vasco a continuar impulsando la capacitación idiomática y didáctico pedagógica del profesorado en lenguas extranjeras a fin de tratar de alcanzar los objetivos fijados por la unión europa para e laño

ekitatearen eta kalitatearen aldetik bikaintasunerantz aurrera egiteko neurri sorta dentro de este plan de mejora como se dijo en la comparecencia

medidas para la consolidación del bilingüismo en el marco de una educación plurilingüe hasta llegar de forma progresiva a la generalización de la oferta de la primera lengua extranjera

bilingüismo y plurilingüismo el departamento promoverá la consolidación del bilingüismo en el marco de una educación plurilingüe que contribuya a la mejora y desarrollo de los modelos lingüísticos vigentes para ello asegurará al euskera el tratamiento preferente necesario para compensar

lenguas oficiales a fin de que el alumnado alcance al finalizar la educación básica una competencia comunicativa

extranjera todo ello sin excluir una segunda lengua en aquellos centros que así lo prevean en su proyecto lingüístico en todo caso se tendrán en cuenta las condiciones socio lingüísticas del alumnado y del entorno en el artículo once el departamento promoverá

y el artículo veinticuatro cita el proyecto lingüístico del centro que dice que se entiende por proyecto lingüístico del centro la planificación de todos aquellos aspectos relacionados con la enseñanza y el uso de las lenguas de cada centro educativo para llevarlo a cabo en su propio ámbito

o al consejo escolar de los centros privados concertados la aprobación del proyecto lingüístico del centro

estratégica que presentó la consejera en cuanto a la autonomía de los centros

el impulso a la escuela pública los datos que ha dado sobre el número de alumnos habría que ver cómo se han medido porque aquí lo importante es el número de centros que cada vez va a más

las madres por tanto existe un decreto que planifica en tres artículos lo que tiene que hacer el gobierno

es una medida pero no puede ser la única trescientos cincuenta centros escolares están ya formando a sus trabajadores

identificar por ejemplo cuáles son los puestos clave cuáles hay que formar

qué hacemos con el que viene nuevo o con la que viene nueva profesora errealitatetik hurbilen dagoen proiektua da hizkuntza proiektua

es decir en el proyecto lingüístico confluyen dos aspectos fundamentales como son el conocimiento y el uso de las lenguas para ello

lo que se denomina la actualización idiomática de los profesores

eta hemen berriro ere aipatu behar da el artículo once del decreto

eta integrala todo esto que he citado se ha presentado ya en la cámara está

si no estará colgado hoy en la red y el departamento lo va a dar a conocer a los centros escolares para dar inicio a esa nueva fase de mejora eskerrik asko

non esaten duen no a la recuperación del euskera como objetivo se gasta mucho y en inglés no se gasta nada eta

esaten duenean are gehiago esaten dut de acuerdo con lo establecido en la carta europea de las lenguas regionales o minoritarias de mil novecientos noventa y dos

favorecen el uso del castellano y que las evaluaciones han demostrado que la utilización del euskera en el proceso de enseñanza aprendizaje resulta fundamental para adquirir una competencia comunicativa oral y escrita suficiente que es lo que dice la ley pero no se consigue esto

investigaciones y evaluaciones que se han hecho este sistema plurilingüe tendrá como eje el euskera con el fin de superar el desequilibrio actual

hoy en día desfavorable para el euskera y promover la igualdad social de ambas lenguas y la igualdad de oportunidades para el alumnado horixe da

guztiz bat gatozena y este es el debate para nosotros este es el debate solamente que el gobierno no ha tenido la valentía de llevar esto que dice desde euskal herria bildu se lo hemos dicho mil y una veces y hemos mostrado nuestra voluntad de llegar a acuerdos pero el gobierno se ha amilanado desde nuestro punto de vista

va a ser el euskera pero por otra parte van a seguir con los modelos vigentes cuando sabemos que los modelos vigentes actuales no garantizan que el eje sea el euskera

denborak erakutsi du y esto me lo reconocerá señor oyarzabal que nos adelantamos por lo menos a lo que es la decisión que tomó el consejo de ministros de europa en el dos mil nueve diciendo que

el nivel referencial tenía que ser el be uno eso nosotros lo hicimos en el

muchas gracias señora presidenta y realmente yo lamento que en una cuestión como esta en la que creo que deberíamos encontrar un punto de encuentro

al inglés en nuestro sistema educativo pues como siempre nos encontremos

de los nacionalistas y en especial de bildu que en este caso siempre es refractario al progreso

en primer lugar lo que proponemos es alcanzar los objetivos estratégicos que fijó la unión europea en el año dos mil nueve para el

una cosa es compartir el objetivo y otra cosa es no hacer nada para alcanzar ese objetivo es que tenemos que hacer más cosas de lo que estamos haciendo para alcanzar ese objetivo y lo que planteamos es simplemente

cumplir con los objetivos señalados en la unión europea y no quedarnos a la cola de europa en este tema en segundo lugar se presente ante la comisión de educación un plan de generalización de la enseñanza del inglés de tal modo que efectivamente se llegue al conjunto del alumnado que no se dispare

atrás a la pública no pueden venir aquí cada dos por tres los señores de eh bildu a decir que defienden la enseñanza pública cuando su posición refractaria a la incorporación del inglés al sistema educativo lo que está haciendo es limitando las oportunidades de todas las niñas y niños

ustedes están limitando sus oportunidades de futuro y qué estamos planteando

revisar la normativa de ayudas a centros claro es que preciso revisar la normativa de ayudas a centros para el desarrollo de esos proyectos trilingües y plurilingües que se están extendiendo

y necesitamos apoyar con recursos y profesorado efectivamente capacitado

reforzando además el seguimiento a esos proyectos es que lo que estoy diciendo no es chino

se empeñan ustedes en seguir estudiando en seguir reflexionando lo que tenemos que hacer con el inglés oiga que llevamos ya que

tomemos en serio este asunto y lo que no es menos importante garantizar una financiación necesaria para la generalización progresiva de esa enseñanza de materias curriculares no basta con dar inglés y lo sabemos aquí

sabemos que no basta con dar el inglés sabemos que no basta con eso sabemos que hay que incorporar el inglés a otras materias

y no los tenemos y nos empeñamos en perder legislaturas en esta cuestión y esta lamentablemente ha sido una legislatura perdida para el inglés pero no podemos hablar

la legislatura anterior sirvió para poner las bases de lo que son todos los proyectos experimentales oiga si hoy hay trescientos quince centros que están poniendo en marcha

en la legislatura anterior y nosotros impulsamos la labor de ese gobierno

en esta legislatura se han recortado no es que no se hayan ampliado se han recortado todas las partidas de apoyo al inglés es que hemos retrocedido no es que estemos lentos en el camino del inglés es que hemos retrocedido es que la legislatura del pnv es una legislatura perdida para el inglés donde se han recortado las partidas

que tenemos que aclarar cómo conseguir alumnos euskaldunes oiga usted cree que en el año dos mil dieciséis la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es cómo conseguimos alumnos euskaldunes

ustedes están ya un poco antiguos en esto oiga que los retos del sistema educativo

que no podemos estar hablando señor de cómo se forma a quién se forma qué hacemos qué hacemos con el que viene nuevo o con la que viene nueva oiga

ya está pensado ya tenía que estar pensado que empezamos con esta historia hace doce años y tenemos que ir a la siguiente legislatura

oiga que no está sacando ya que nos está sacando ya ventaja todas las comunidades

delante de ceuta y melilla es que esto es una vergüenza para nuestro país es que nosotros no podemos permitir

limitar de esta manera las oportunidades de futuro de los jóvenes vascos es que no puede ser es que bildu está en este caso lo hizo y también hoy la señora presidenta con la alta velocidad

porque bildu se empeñó en que no quería la alta velocidad y como el pnv siempre está

hace poco vamos tarde con eso vamos a estar a la cola con el inglés porque

le molesta el inglés en el sistema educativo y en este caso el pnv no da ningún paso

que además en este caso se esté perjudicando a todas las familias que llevan a sus hijos a la escuela pública se les está limitando la posibilidad

de las empresas vascas exigen el inglés para optar a un puesto de trabajo el cuarenta por ciento

será la mayoría de las empresas vascas las que exijan inglés y la mayoría señorías la mayoría de los alumnos y alumnas que hoy cursan en la enseñanza pública sus estudios

de unos años la etapa obligatoria no tendrán capacidad en inglés para optar a esos puestos de trabajo

ha sido han hablado de la necesidad imperiosa del inglés

necesidad pero señor maneiro eso probablemente no se lo haya contado yo personalmente pero ha de saber que desde que

el objetivo de barcelona dos mil dos que se reitera por parte de la unión europea en dos mil nueve cuando nosotros entramos a gobernar pusimos en marcha lo siguiente

yo misma fui a la comisión de educación para poner en marcha todo el sistema del marco y de educación trilingüe que se inició el curso siguiente es

pero además pusimos en marcha lo siguiente estancias semanales para

idiomático en sexto de primaria en bernedo y berriz becas más de dos mil para estancias de cuatro semanas en julio y agosto

secundaria y profesionales duplicamos el número de auxiliares en los centros educativos auxiliares de conversación que traíamos nativos de la lengua que queríamos enseñar es decir

mucho muchísimo en el tema del inglés muchísimo con el respaldo como usted bien sabe del grupo popular pero

eso que se hizo es lo que ha permitido que el

que tenía asimismo algunas otras iniciativas iniciadas antes que el sistema concertado y el sistema de ikastolas tengan su propio motor porque señor agirrezabala no me va a decir usted que las ikastolas

es que el euskera y el inglés no dan suma cero es justo

y usted sabe que por la situación social lingüística de esta comunidad con una fuerte diglosia

más que a la historia en la situación social lingüística de esta comunidad en la cual

del alumnado que tenemos es de origen euskaldun no podemos esperar a la puerta de la tienda a que todo las dos lenguas cooficiales que no hay que mirar de ninguna de las maneras en términos de utilidad con el inglés porque las dos lenguas cooficiales

lleguen hasta la superación completa para empezar con el inglés a usted mismo le oí el otro día decir que

debieran tener un be dos en euskera y en inglés dijo usted oiga pues mire la manera de conseguirlo en euskera y en inglés be dos

que lo reitera en dos mil nueve pero además mire usted es que este gobierno dice

tendrá en trilingüismo desde primaria a bachillerato el curso que viene y esto está fechado

pero es que en los datos como nos dice la señora mendizabal naturalmente y afortunadamente

van mejorando pero es que necesita la escuela pública un impulso importante a este respecto porque los datos que hemos aportado aquí humildemente

y en esos datos del gobierno tal y como nosotros nosotros dejamos ciento dieciocho centros

la enseñanza trilingüe luego nos encontramos en dos mil catorce dos mil quince con ochenta y dos en la pública y ciento setenta y dos en los concertados y ahora nos encontramos según respuesta del propio gobierno con ciento diez públicos y doscientos cinco privados concertados

cincuenta y ocho mil y pico oiga es que el alumnado de la concertada

al de los centros públicos oiga esto requiere una llamada de atención

de la que es titular del que es titular del gobierno del que es titular de la pública dificultades claro

y que la gestión del sistema educativo era fácil quién lo dijo nadie nadie todos lo sabemos pero eso no puede pararnos

el euskera y el inglés no están de espalda es al revés es justo al contrario es decir un alumno bilingüe tiene muchísimas más posibilidades de aprender la tercera lengua sea esta en inglés o sea esta el euskera tenemos que

importante un esfuerzo seguir con el esfuerzo importante

la comunidad tendrá que hacer porque la escuela es la que ha hecho el mayor esfuerzo pero lo que no tenemos es ese gran impulso

necesitamos una vez más el esfuerzo de todos pero sobre todo el impulso claro contundente de proyecto de la titularidad

citar en la comparecencia de los datos del met ya dije

suecia y lo voy a repetir es el índice de competencia en inglés a nivel mundial a nivel mundial españa está en el número veintitrés

españa está en el número veintitrés y dentro de españa la comunidad autónoma del país vasco es la primera comunidad que aparece en la lista seguida de navarra

a nivel mundial aparecería detrás de austria en el puesto número once y españa está en el número veintitrés o sea que solo como anécdota porque parece que aquí solo hablamos euskera o solo hablamos castellano bueno upyd y pp

porque se ha incrementado muchas partidas relacionadas con las lenguas extranjeras

todas esas partidas que ha citado usted señora celaá además este gobierno las ha aumentado y no las va a encontrar como las dejó agirrezabala jauna nik

qué sentido tiene pedir al gobierno un plan dentro del plan dentro de ese plan parece que estamos hablando de muñecas rusas una muñeca dentro de otra un sinfín es un plan dentro

realizado por la consejera celaá decimos que no tiene sentido porque tenemos

medidas efectivas el gobierno ha realizado un intento sincero

no podemos esperar tres meses a que se presente el plan que solicitan en la propuesta

tiene que estar preparado ya para que los centros tengan conocimiento de lo que se les viene y hagan los preparativos necesarios para el curso próximo tiene que estar ya ustedes están intentando ralentizar el trabajo de la administración no podemos entender sino lo que quieren planteamendu hori hobetzeko planeko

gobernuak helburu horiek bideratzeko como he dicho al principio el departamento ya ha presentado el plan de mejora y los objetivos y líneas estratégicas que se van a trabajar

dinamizar o ralentizar el proceso no podemos

porque no serían tres meses sería un curso completo al gobierno le podemos decir qué pero no cómo

en la red concertada y muy sustanciosamente un impulso potente dio buenos impulsos para el met en la concertada

o que la pública no le seguía la pública está aumentando y hay un montón de directores que están trabajando para

la evaluación del met es muy valiosa señora celaá estoy muy de acuerdo con usted la evaluación científica de los datos nos dice que

es el aprendizaje del inglés fuera del met ante

las dos lenguas oficiales y la introducción del inglés porque unas lenguas

navarra nafarroa valencia cataluña y nosotros

extranjera va más lento y eso es normal porque nosotros tenemos un sistema de dos más dos dos lenguas oficiales más dos lenguas extranjeras en cambio en otras comunidades solo tienen una más dos entonces nosotros queremos llegar a la fórmula dos más dos obviamente puede retrasar el ritmo

es mayor pero a la vez es una ventaja porque el saber dos lenguas te ayuda para que las competencias lingüísticas

quiero citar como ya no tengo tiempo señora celaá en el último informe

replantear la educación hacia un bien común es el que sigue

realizar el curriculum del dos mil siete y en el dos mil diez usted

entonces digo el informe de la unesco del dos mil quince dice

que el curriculum del país vasco va en la línea de las competencias que necesita el alumno porque aparte de matemáticas y contenidos hay que aprender a pensar a aprender a emprender a exponerse oralmente por escrito y digitalmente la competencia es mucho más global
no queremos alumnos cojos con inglés amaitu no hay que hacer risas del heziberri por favor y siendo usted consejera o exconsejera menos todavía no ridiculice amaitu mendizabal andrea el sistema educativo vasco ha sido citado en el informe unesco de dos mil quince y ya sabemos que el mundo globalizado eskerrik asko mendizabal andrea nos va a pedir

nos dice a usted a nosotros señor oyarzabal que somos refractarios a la incorporación del inglés

que le quede muy claro nosotros queremos que los niños y las niñas al acabar la educación obligatoria sepan euskera castellano inglés y si es posible

o sea que le quede muy claro porque usted tiene aprendido y lo repite cada dos por tres que eso es así

por lo tanto que le quede muy claro y vamos a hacer un ejercicio práctico

vamos a establecer qué niveles competenciales tienen que conseguir los alumnos y las alumnas al acabar la educación secundaria obligatoria en mi primer turno hacía referencia

en contra pero vamos a ver un poco lo que dice la evaluación

vamos a coger lengua por lengua castellano y en castellano dice

prácticamente todos y todas consiguen el be uno y los alumnos de educación secundaria en tercera de la eso consiguen el be dos no hay ninguna diferencia entre

vamos al euskera y en euskera tenemos la siguiente situación en función del modelo en el modelo a en primaria los alumnos justo consiguen el a dos en el modelo b en primaria el sesenta y siete coma tres consiguen el be uno

el be uno lo consiguen el setenta y ocho por ciento vamos a la secundaria en euskera el modelo a recomienda el grupo de trabajo que se podría conseguir al acabar la educación secundaria obligatoria el be uno recomienda que los del modelo b bueno recomienda que el be dos sería la referencial pero que los del modelo b

por lo tanto aquí tenemos un déficit si planteamos

los mismos objetivos para las dos lenguas oficiales imagino que en esto estaremos de acuerdo si estamos de acuerdo hay un déficit porque los alumnos y las alumnas que están el sistema educativo vasco no

por lo tanto aquí habrá que hacer algo vamos al inglés y en el inglés tenemos por una parte en primaria

ya sabe usted tal y como nos dijo la consejera que habían hecho tres controles uno el inglés plus dos y tres el inglés obligatorio es decir lo que marca el decreto como mínimo que tiene que trabajar el inglés y ahí tenemos que en primaria

y los del inglés obligatorio un trece por ciento y en secundaria tenemos tomando como referencia el be uno que el noventa y uno por ciento lo consiguen los que están en el inglés plus el setenta y cinco coma uno por ciento los que están en el met

en lo que es el inglés obligatorio las tres cuatro horas en función de la etapa que es lo que marca el currículum como mínimo por lo tanto tenemos aquí dos retos

euskera e inglés y ustedes por eso decía yo anteriormente la pregunta es cómo conseguimos

en euskera be dos castellano be dos inglés

la escolarización obligatoria cómo lo hacemos ustedes plantean un sistema veinte veinte veinte el met eso es el met y aquí están de acuerdo

ha hecho alusión a las ikastolas no solamente las ikastolas hay colegios públicos que tienen

un mínimo de un sesenta por ciento señora celaá que es lo que nosotros planteábamos y yo creo que puede ser un elemento

analizar porque lo que sí está claro es que las evaluaciones lo que dicen es

de presencia vehicular en la escuela con respecto al euskera el éxito está bastante garantizado y nosotros se lo planteamos a usted y usted dijo que no

por lo tanto por qué no podemos hablar de esto de establecer un sesenta por ciento como mínimo de euskera en las escuelas

en el castellano de adquieren tanto en primaria como en secundaria en todos los modelos

vemos cómo se introduce el inglés de una manera vehicular que nosotros en eso estamos de acuerdo en la introducción de manera vehicular del inglés señor oyarzabal

que estamos de acuerdo por lo tanto nosotros creemos que este es el planteamiento y yo creo que una

ardura lo que vemos es que el departamento no asume

y lo que le queremos hacer entender al departamento de salud es que externalizar la gestión de un servicio no implica que tenga que externalizar la responsabilidad del servicio público en este caso del transporte sanitario

porque él el departamento de salud tiene que dar cuenta a la ciudadanía tiene que responsabilizarse ante la ciudadanía y es lo que vemos que falta es lo que no hace eta badirudi paperak

ez dira behar bezala bideratzen eta abar luze bat y mientras qué mientras qué está pasando pues lo que está pasando es que la ultima adjudicación

y mientras no se resuelva la cuestión para que se siga prestando el servicio

a las empresas que siguen trabajando en dicho sector

la mejora de la calidad del servicio se sigue sin hacer un seguimiento exhaustivo etcétera etcétera se sigue sin mejorar los recursos humanos

y luego hablamos de la optimización de recursos y la buena gestión del dinero público

legebiltzarkideok sailburuok egun on denoi señorías lo que nos trae hoy aquí esta moción es una vez más la preocupación

es verdad que hemos conocido esto en bastantes ocasiones a través de diferentes comparecencias sobre todo de los representantes de los trabajadores en comisión de salud pero también del departamento para hacernos

una idea general de lo que está ocurriendo en el sector la verdad es que

que se recogen en el acuerdo del siete de abril del dos mil catorce

pero no queremos quedarnos ahí sencillamente en aprobar lo que ya aprobamos antes porque los recortes las dificultades de los trabajadores están ahí

porque rebajan su oferta para conseguir la adjudicación rebaja que se traslada automáticamente a las condiciones de trabajo de los trabajadores de esas empresas

primero por insuficiencias del propio número de ambulancias lo que significa esperas insoportables en algunos momentos atenciones inadecuadas que pueden llevar a perjudicar la vida de los pacientes también carencia de material de trabajo adecuado se nos ha informado uniformes gorros calzado insuficiente que puede afectar

trasladados en esas ambulancias sin la debida limpieza

también es incorrecta la organización interna de las bases donde radican los trabajadores porque nos han relatado la existencia de circulaciones cruzadas entra la atención a la limpieza

que se mezclan con la limpieza y asepsia de los utensilios personales se limpian las bateas utilizadas por los pacientes en el mismo lavabo y con los mismos trapos que

los platos en los que comen lo cual nos parece unas condiciones de trabajo absolutamente no queremos seguir enumerando más barbaridades que las hay por lo tanto buscando que es lo que buscamos siempre la mejor

posible a los pacientes y el derecho a la protección de la salud y eso lo recogemos como he señalado antes en el acuerdo de transacción también nuestro primer punto

intensificar la vigilancia y seguimiento de las cláusulas del convenio pero también le pedimos a la inspección que como centro sanitario que es y dado que depende de la autoridad sanitaria que tiene el departamento de salud que compruebe que un centro sanitario reúne los requisitos tanto en su dotación como en su organización interna para ser autorizado a mantener un servicio sanitario por eso

se recoge la necesidad de la vigilancia por parte de la inspección sanitaria y finalmente el otro punto

es la falta de condiciones de trabajo semejantes para todos los trabajadores y es la búsqueda de un convenio autonómico es verdad

ni del de salud el alcanzar un convenio autonómico pero sí impulsar

departamentos para que busquen acciones que ayuden a la

de las condiciones de trabajo porque como digo

es la otra segunda gran preocupación de los trabajadores finalmente señalar

pero sí las condiciones de los concursos el concurso sale

acepta que elige que valora y aprueba el departamento de salud y deseamos que la responsabilidad económica que las cláusulas que valoran

porque como ustedes saben la valoración económica tan importante incentiva las rebajas de las empresas que solicitan participación en el concurso

la empresa adjudicataria que se lleva la adjudicación por ser la más barata traslada inmediatamente en una disminución de calidad tanto de las condiciones de los trabajadores

por ello señalar que efectivamente queremos que el departamento de salud y de

más activamente en mejorar las condiciones primero en las que salen los concursos y segundo impulsar

autonómico finalmente felicitar a todos los portavoces de los grupos parlamentarios que han hecho un gran esfuerzo para alcanzar este acuerdo que puede contribuir a mejorar la asistencia sanitaria y la protección a la salud que

y brevemente porque hay un acuerdo y nosotros no vamos a sumar todos queremos ese acuerdo digo el convenio económico y desde luego

instando a que se trabaje por él estamos hablando de transporte sanitario

planteamientos desde la propia administración y yo creo que objetivamente podemos ver que se va avanzado ya el hecho de que se haya hablado de esa cuestión

tiene una voluntad de avanzar en un camino adecuado y yo creo que

tenemos que tener en cuenta que son miles y miles de servicios diarios mensuales todo tipo de transporte sanitario de todo tipo y que

algunos transportes fallidos o defectuosos en algún caso pero creo que son la inmensa minoría de lo que se produce

en este transporte sanitario en el país y desde luego hay que referirse a los hechos y

denuncias que se plantean yo creo no hay que pensar que

y esa es nuestra voluntad en relación

algunos problemas de servicio entender que puede haber algunos problemas

demandas sindicales por ahí que también se les trasladan como siempre al parlamento pero en cualquier caso yo creo que la voluntad y eso lo tengo que reconocer

y desde luego hacer un planteamiento y seguir haciendo unos planteamiento en los términos que dice esta iniciativa nosotros ya lo abordamos en la iniciativa del siete de abril

de la transacción uno de los puntos de la iniciativa del siete de abril en relación con la reforma laboral no fue

dejó constancia en aquella comisión y en aquel texto aprobado

que describen la iniciativa planteada por los grupos y a la que nosotros nos sumamos pues bueno tienen que ser aceptado por nosotros desde luego no cabe duda de que en la medida de lo posible viendo que

de las que estamos hablando y viendo que esa labor también depende de no solamente de las empresas sino de lo que haga la administración

del cumplimiento de las cláusulas nunca está de más es decir lo tiene que hacer hay que intensificar

que se está haciendo pero en cualquier caso si hay que intensificar porque hay algún defecto porque hay un transporte fallido porque hay alguna condición que se pone entredicho

y que se analice para que en el caso de que no se cumplan las medidas oportunas y las condiciones exigidas

en el caso del transporte sanitario como en el caso de cualquier otro servicio

la administración sanitaria lavanderías los comedores

los electricistas cualquier empresa que trabaje tendrá que cumplir

bien auditadas y bien inspeccionadas pero en cualquier caso que se diga que intensifique está bien dicho y nosotros

en ese ámbito de la colaboración interinstitucional efectivamente están bien llamados los dos departamentos

a realizar a quien se contribuyan a esa homogeneización de las condiciones

y en relación con el convenio autonómico pues es un objetivo lógico es un objetivo que estamos ahora más cerca de alcanzarlo

valorar el segundo punto de la enmienda de transacción y decir que nosotros votaremos a favor vuelvo a decir en una de las cuestiones que fue planteada en la proposición no de ley de siete de abril no estamos de acuerdo pero

intensificar la inspección y a conseguir ese convenio definitivo muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aiartza jauna zurea da hitza

por un lado su texto original el texto de la moción por otro su discurso su texto de moción

sorprendente a mi juicio y por calificarlo de alguna manera sorprendente y desde las enmiendas del resto de los grupos entiendo que

y realmente me alegro su discurso su discurso ya

quizás porque esté un poco más acostumbrado tanto el discurso que realizó en la interpelación el discurso que hemos escuchado hoy como a los que ha realizado en algunas otras ocasiones sobre esta cuestión con una metodología clara en su discurso

esto nos preocupa mucho nos traslada una imagen esto no funciona no se ha hecho nada utiliza pequeños datos a modo de ejemplo que parecen demostrar esa afirmación y recalca para finalizar no funciona no se hace señora ubera

una falsa imagen que no soporta el más mínimo análisis no soporta el análisis hoy

al sailburu de empleo y no soportó el más mínimo análisis en sus solicitudes de comparecencia

de mayo y de septiembre de dos mil quince y mi objetivo de hoy es constatar esa evidencia centra usted el debate en el cumplimiento

y qué le puedo decir al respecto pues fundamentalmente dos cosas que se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo y que este cumplimiento está constatado dos cuestiones introductorias por un lado como todos sabemos el transporte sanitario se trata de un servicio que desde sus inicios

no de la cartera común básica por otro centremos la responsabilidad del gobierno que la tiene la responsabilidad del gobierno

es realizar el seguimiento de la prestación del servicio y garantizar la calidad su calidad la calidad del servicio qué nos plantea el acuerdo

tres puntos primero seguimiento del cumplimiento efectivo de las condiciones recogidas en los pliegos segundo impulsar y encauzar el convenio autonómico y en tercer lugar unas medidas transitorias mientras no haya convenio autonómico

en los puntos uno y dos y de qué está hablando este acuerdo el acuerdo está hablando fundamentalmente de calidad en la prestación del servicio y qué es la calidad

que la calidad es el resultado de la interacción de dos dimensiones la dimensión subjetiva lo que la o el usuario quiere sus expectativas y la dimensión objetiva lo que se ofrece el servicio que se presta siguiendo este esquema se puede prestar

con percepciones diferentes de los usuarios respecto a su satisfacción

esta percepción subjetiva tendremos que realizar una proyección estadística datos señora ubera encontramos dos partes en el acuerdo

referida a la verificación del seguimiento efectivo y las medidas inmediatas de corrección en el caso de incumplimiento en su dimensión objetiva es una prestación adecuada con servicios con recursos proporcionados

en condiciones de equidad y que es suficiente y sostenible con calidad valorada con criterios de objetividad de un servicio de alta utilización por parte de nuestra ciudadanía basado en ítems concretos puntualidad rapidez seguridad limpieza

trato recibido datos señora ubera datos datos con seguimiento y control efectivo a través del trabajo de funcionarias y funcionarios públicos de la inspección de los servicios sanitarios control público

se han ido comunicando a todos los grupos parlamentarios en comisión y en plenos de control un dato a modo de resumen medio millón decía el señor barrio muchísimas medio millón de servicios durante dos mil quince medio millón quinientos mil servicios ciento setenta quejas

datos conclusión se trata de un servicio de alta calidad y se percibe por la ciudadanía y especialmente por las y los usuarios

aun así el departamento sigue trabajando en áreas de mejora la segunda parte del acuerdo las condiciones laborales de las personas que prestan este servicio entendemos que también son parte de la calidad del servicio y no dude que la calidad de las condiciones de trabajo es otra cuestión por la que este gobierno vela en este caso en coordinación el departamento de salud con el departamento de empleo

eskerrik asko mahaiburu andrea en relación a esta segunda cuestión quiero dejar constancia de dos realidades

con una alta diversidad de empresas proveedoras cada una de ellas con convenios diferentes

por otro lado el ámbito competencial este gobierno no mira hacia otro lado en esta cuestión señora ubera pero ni el departamento de salud

por mucho que usted repita malintencionadamente y les llame patronal hoy también

y cuál es esta responsabilidad es colaborar para poder ayudar a que las partes legítimas los representantes de las y los trabajadores y los representantes de las empresas lleguen a acuerdos en la línea del mandato parlamentario materializado

esta responsabilidad en reuniones preparatorias reuniones con una sola parte reuniones con ambas partes

esa ayuda de un tercero cualificado de la que nos hablaba el sailburu toña datos y sobre esta segunda parte también le han dado datos nos han dado datos le recuerdo las últimas reuniones de dieciocho de noviembre del quince tres de diciembre del quince veintiuno de diciembre del quince siete de enero del dieciséis catorce de enero del dieciséis veinte de enero del dieciséis veinticinco de enero del dieciséis tres de febrero del dieciséis y después de su interpelación

datos que dejan constancia de que el mandato parlamentario se está cumpliendo y se está cumpliendo con altos niveles de calidad

todos sabemos que la calidad es un objetivo constante por ello nosotros escribimos al presentar nuestra enmienda a su moción

seguir articulando medidas hacia el convenio autonómico al entender cumplido hasta hoy el mandato pero sabemos que hay que seguir en la constancia de ese cumplimiento

sin más quiero aprovechar la ocasión para reconocer al gobierno por el cumplimiento de este mandato parlamentario y para animarles en la seguridad de que así va a ser

sí presidenta muchas gracias no efectivamente yo me he referido antes también no cabe duda de que hay que poner en valor las quejas digo de los sindicatos o de

a este parlamento y han puesto sobre la mesa algunas llamaba antes pues algunos

o con problemas incluso de tiempo era una cuestión yo me refería a que no es no hay quejas masivas por parte de los usuarios no hay quejas el número de quejas importantes es decir cualitativamente importante por parte de los usuarios por parte

los servicios y en ese sentido hay que reconocer que lo que sí hay es bastante contento bastante bienestar

quejas que efectivamente los usuarios los pacientes denunciasen determinadas prácticas pero vemos que por ese lado por ese lado que también hay que ponerlo de manifiesto no es cualitativamente importante el número de quejas es cierto que

los sindicatos fundamentalmente y de las personas que trabajan en esas empresas algunas han sido llamativa desde luego porque no respondían a criterios de calidad total entendemos que también pueden ser disfunciones que es lo que el departamento y la inspección tiene que arreglar pero yo creo que en definitiva yo creo que hay algo que

circunstancias hacen que álava bizkaia y gipuzkoa las condiciones sean algo distintas lo hayan sido históricamente

yo creo que estamos por el buen camino yo creo que no hay que alarmar hombre lo ha dicho la señora ubera claro que bildu quiere que todo sea público pero claro lo vemos día a día

todo es hacía la gestión pública directa y más y más yo creo que

que se tiene en la sociedad muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria aiartza jauna zurea da hitza

hablando de realidades efectivamente una realidad es que

una herramienta que entendimos buena y que seguimos entendiendo buena

hoy es que se constata el cumplimiento del acuerdo si bien este acuerdo tanto el del dos mil catorce

si hay algo que el departamento de salud nos da en la comisión de salud son datos son datos no le voy a hacer

al diario de sesiones pero ahí lo tiene datos datos y más datos

y de su equipo otra realidad es que se sigue garantizando la calidad y se sigue garantizando la calidad en el ámbito de la verificación de las condiciones recogidas en los pliegos

garantizando la calidad en el ámbito de la ayuda

sin ninguna duda señora ubera y referido al diagnóstico que nos comentaba nos hablaba de un diagnostico una imagen que trae el sector

el gobierno una imagen del sector una imagen del gobierno hay otra imagen más importante que esta y que esta seguramente

de la ciudadanía de los usuarios de los usuarios esa es la imagen y desde la humildad pero con los números

satisfacción con el servicio noventa y tres coma veintisiete por ciento muy satisfactorio

y los trabajadores noventa y siete coma cincuenta y cuatro muy bueno bueno trato humano trato humano en la prestación de ese

coma ochenta y nueve esa es la otra imagen señora ubera esa es la otra imagen una imagen real y

presento en nombre del grupo perdón quería dar la bienvenida y agradecer la presencia de los miembros de la asociación de víctimas del amianto de euskadi

decirles que presento en nombre del grupo popular esta proposición no de ley por la que instamos al gobierno vasco

que contenga medidas plazos y asignación económica necesaria para su ejecución

asociación igual que conocemos en esta cámara por darles algunos datos según la asociación de víctimas del amianto de euskadi entre mil novecientos sesenta y cinco y mil novecientos ochenta y cinco

fue cuando se importó más amianto en nuestra comunidad autónoma se tiene constancia que a mediados de los setenta del siglo pasado llegaron a ser en torno a cien mil toneladas de amianto la mayoría de los edificios

y mil novecientos ochenta y cinco contienen amianto bien en sus elementos de construcción o en sus instalaciones mucho de este amianto habrá desaparecido pero todavía hoy podemos encontrarlo edificios e instalaciones industriales el problema del amianto afecta a la población vasca hablamos de un número importante de trabajadores

según osalan desde la asociación estiman que este dato no es real

incluidas dentro de estos datos bien trabajadores expuestos de forma indirecta o ocasionalmente o

medioambientalmente por la sustancia y tampoco sabemos ni se conocen tampoco la asociación los criterios que osalan maneja para elaborar este

o las mutuas de accidentes de trabajo pero estos registros no reflejan la realidad osalan también en su informe sobre el amianto el daño de la exposición al amianto tiene un periodo de latencia y treinta años nos dice o incluso más por lo tanto estamos en un momento crucial y que requiere de los mayores esfuerzos

ya registrados y también a los indirectamente afectados por exposición mínima

excepcional afectados que dudamos de que estén registrados y que están fuera de los controles hay un dato que llama poderosamente la atención según los datos de cepross de seguridad social que es

agente causante y comunidades autónomas el dato es de dos mil catorce en el país vasco la tasa de cáncer por enfermedad profesional

reconocidos es de tres coma veintiocho triplica la tasa media de toda la tasa media solo se han registrado estos casos comparables significativos de cáncer en nueve comunidades autónomas y el país vasco está a la cabeza con una amplísima y llamativa diferencia este dato que es orientativo

y así lo dice osalan que dentro de los próximos cinco años estaremos en el punto álgido de esta enfermedad

y aún no estamos en el punto álgido entendemos desde el grupo popular que es necesario

para atender de la mejor manera posible las necesidades de los afectados me refiero a actuaciones que desde el gobierno vasco se deben de poner en marcha que son parte de las reivindicaciones que la asociación de afectados por el amianto como les decía antes

también en esta cámara y hace muchos años como decía el anterior gobierno ofreció a la asociación de afectados por el amianto la elaboración de un plan del amianto un plan

los daños causados por el amianto desde el gobierno son varias las medidas que se pueden aplicar y de distintos departamentos poner más alerta sobre el amianto sobre los afectados

salud y medio ambiente desde la consejería de trabajo entendemos que hay que actualizar el registro de empresas que

amianto solo hoy están registradas las empresas que se ocupan de los protocolos de desamiantado osalan ya advirtió en la ponencia que hemos tenido sobre el amianto

en muchísimas empresas que no están registradas también

en los listados de trabajadores que han podido estar expuestos al amianto

seguimos insistiendo en la elaboración de un mapa de amianto a partir de los casos detectados esto es posible hay quien dice que no es posible sí es posible se puede hacer un mapa de suelos contaminados también especificar en esos suelos contaminados cuáles son suelos con amianto y también se puede un mapa de amianto a partir de los casos detectados podemos reforzar campañas de información sobre esta problemática del amianto en grupos que potencialmente han podido estar expuestos mayor vigilancia en las obras de rehabilitación

elevar las sanciones por incumplimientos de protocolo en labores de desamiantado desde la

hacer más cosas mayor coordinación con osalan para aplicación de los protocolos de vigilancia sanitaria específica post ocupacionales

que creemos que no se están haciendo las revisiones y los protocolos establecidos

protocolo ante nuevos casos de afectados de amianto y enfermedades

y como les decía mayor coordinación con osalan y el instituto de la seguridad social en los datos en el departamento de vivienda también se pueden hacer cosas el control en las licencias de obras de rehabilitación en edificios y además edificios también que están abandonados y que desconocemos

y si realmente tienen grados de contaminación o no hay zonas en la comunidad autónoma del país vasco

siente temor a lo que en algunos edificios abandonados hay desde medio ambiente también se pueden hacer

y como les decía antes la elaboración del mapa de riesgos por lo tanto nosotros insistimos

que como forman parte de las reivindicaciones que la asociación de afectados hizo a esta cámara que atendimos

trabajar para la creación o posible creación de un fondo de compensación para estos afectados hemos hecho la ponencia que esa

que las conclusiones fueron aprobadas en esta cámara en junio de dos mil quince y que ahora nos queda otra fase que es la fase que contempla medidas para que el gobierno vasco amplíe que no décimos que no haga nada pero se puede ampliar y mejorar

tratar de que se elaboren y se hagan los registros con mayor rigor

que también sobre las empresas se ponga un énfasis importante igual que en los edificios construidos en determinada época y que sospechosamente

por lo tanto señorías como les he relatado hay una serie de cuestiones que entendemos que son necesarias

y salvo el partido socialista que no ha hecho mención en su enmienda tanto el grupo nacionalistas vascos como

coinciden con nuestra idea el grupo nacionalistas vascos dice que hay que hacer un plan de prevención y reparación para los afectados por el amianto lo dice en su enmienda

desde bildu dicen que también esto podía estar recogido en un instituto específico

el grupo socialistas vascos dice que bueno que madrid cree el fondo y se olvida de alguna manera de lo que se puede hacer en esta comunidad autónoma y de lo que se puede instar al gobierno y aparentemente

porque si el grupo nacionalistas vascos dice que hay que hacer hay que avanzar en la preparación de un plan de prevención y reparación para los afectados por el amianto

desde el grupo popular pero cuál es la diferencia señorías cuál es la diferencia nosotros el grupo popular proponemos que ese plan

que lo haga el gobierno de españa un plan para qué

para que le diga a empleo y trabajo lo que tiene que hacer

devolvemos las competencias al gobierno de españa o es que los días pares nos toca decirle a españa que nos haga las cosas

pedimos mayor competencia vamos a ver

es fantástico es fantástico desde luego como

pero de verdad de verdad creo que este gobierno puede hacer cosas las debe hacer debe ampliarlas

y creo que no debería tener mayor problema en adquirir un compromiso con los afectados por el amianto creo que se lo debemos

lo necesitan y es nuestra obligación y nuestra responsabilidad también como gobierno con una capacidad de ejecución por lo tanto no entendemos por qué de repente el grupo nacionalistas vascos en la enmienda de transacción ya se olvida del plan se olvida no hay que hacer un plan ahora ya no el caso es

echar balones fuera y despreocuparse de la necesidad de las necesidades que tienen estos afectados y que como gobierno y desde distintas áreas tenemos unas responsabilidades espero

les parezca oportuno apoyar la iniciativa original nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz andrea isiltasuna mesedez

bien la iniciativa que nos presenta hoy la señora lópez de ocariz tiene desde luego una virtud no pequeña

que esta cámara viene sosteniendo a través de ponencia desde hace dos legislaturas además de otros muchos episodios en los que se ha tratado el tema del amianto y la problemática que de él se deriva y digo que no es menor la virtud de su iniciativa

una vez concluido los trabajos de ponencia elaborado el informe de conclusiones viene el qué hacer después como usted sabe señora lópez de ocariz

la ley que regula el fondo de indemnización para las víctimas del amianto que podrá constituir en un momento dado

esquemático de lo que podía ser un texto articulado porque en definitiva

es llevar adelante una iniciativa legislativa que aboque en la creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto eso es

lo que nos han pedido las víctimas en primer lugar

absolutamente todas las comparecencias en este tiempo han tenido también lugar en sede de ponencia fondo

comparable al que existe en francia en bélgica en italia estados unidos alemania suecia japón es decir los países desarrollados que han vivido esta problemática

determinaron que finalmente la fórmula de resarcimiento y de indemnización del daño se

y nosotros después de haber escuchado a unos y a otros como sabe hemos elegido el modelo francés que además por tradición y cultura

mejor podría aplicarse a nuestro ordenamiento jurídico efectivamente en todas las comparecencias ha habido además otras propuestas y ha habido otras

dos mil once dos mil catorce sí se contenían aspectos relacionados con un plan vasco de amianto en el que se desarrollaban una serie de cosas yo no sé a día de hoy el gobierno

que ha ido dándole continuidad a todas las cuestiones relativas al asunto

le he escuchado a usted y también a los damnificados que hay algún problema

pero tengo entendido que ese problema descansa sobre el hecho de que la inscripción tiene que ser voluntaria porque luego esos trabajadores van a verse sometidos a pruebas médicas algunas de ellas complejas y se necesita su consentimiento personal y tengo entendido que esa es la razón objetiva por las cuales hay algunas solicitudes que no han sido admitidas

y cuyo objetivo fundamental es llevar a cabo una iniciativa legislativa

por elevación al congreso de los y las diputadas porque esos fondos como hemos podido ver tienen un carácter estatal o nacional como se prefiera y por lo tanto lo que usted plantea

poca prevención pueden tener pero sí hablamos de la reparación

excede en mucho a la posibilidad de que pueda hacerse en un ámbito autonómico y yo creo que esto es fácil de comprender por muchas razones de todo tipo la propia

rotación de los trabajadores la dificultad para esclarecer dónde pudieron contraer la enfermedad o dónde se expusieron esos fondos han sido creados con alcance estatal y por lo tanto lo que de esta cámara surge es la posibilidad

de que esa reparación solo pasa por la creación de un fondo de esa naturaleza

un acuerdo de transacción con el partido nacionalista acuerdo de transacción que solo es posible porque teníamos una enmienda porque me ha parecido entender que ha dicho que no teníamos enmienda sí que la tenemos

facultad de hacer una enmienda de transacción con el partido nacionalista vasco

de que aunque haya otras acciones a llevar aunque se pueda mejorar en cuestiones relativas a la seguridad y salud en el trabajo a las medidas preventivas sabe usted que el amianto ya no se comercializa ni se fabrica por lo tanto

sobre esos aspectos han quedado desfasadas porque ni se fabrica ni se distribuye ahora la problemática tiene que ver sobre todo con las tareas de desamiantado y eso también

técnicas de prevención el propio reglamento que descansa sobre la ley de prevención de riesgos

hay una serie de actividades que por supuesto serán mejorables pero yo lo que le invito señora lópez de ocariz es a que no erremos el tiro a que no desenfoquemos

y es que se lleve a cabo una legislación que cree un fondo de esa naturaleza y por eso el acuerdo de transacción que tenemos con partido nacionalista bueno insta al gobierno del estado a la elaboración de un proyecto de ley probablemente el gobierno del estado no va a hacer un proyecto de ley por eso será necesario que nosotros llevemos a cabo esa iniciativa que tenga por objeto la creación de un fondo de compensación para los afectados por los daños derivados del amianto y se propone como esquema a desarrollar el sistema fiva en la actualidad implantado por el estado francés

creemos que eso es donde debemos digamos nuclear nuestro esfuerzo

actividades o mejorar las existentes lo han pedido otros grupos yo no sé en este momento exactamente ni siquiera ha hecho tampoco preguntas concretas

lleva su marcha donde nosotros hemos querido volcar el esfuerzo y centrarnos es justamente en esta demanda esta demanda tan ampliamente solicitada

y esa es la razón por la que nosotros hemos llegado a esta transacción no es óbice para coincidir en algunas de las cosas que usted ha dicho

fundamental nuclear y precisar el objeto de todos estos trabajos que hemos hecho y se concretan en esta enmienda de transacción nada más eskerrik asko itxaso jauna

eta hori da sinatutako erdibidea ikusi eta gero batzuek egin nahi dutena y tenemos muy claro que hoy de nuevo estamos hablando de un tema

otros gobiernos para quedarnos con la conciencia bien tranquila

en muchas hasta el año dos mil treinta el número de enfermos y enfermas enfermas que también las hay

van a seguir aumentando porque el periodo de latencia como ha dicho otra portavoz

es de entre veinte y treinta años es una enfermedad que mata despacio

y la única opción que tienen las enfermas y los enfermos es acudir a la vía judicial sabiendo que es un proceso costoso y lento pero hoy por hoy no tienen otra alternativa personas que fallecen antes de conseguir que se le reconozca la enfermedad profesional como es el último caso del trabajador

agertzen da por tanto consideramos interesante la creación del instituto vasco del amianto para que elabore ese plan de prevención y reparación

y además creemos que ese instituto debería de controlar los registros del amianto instalado

un centro de referencia que aunase sinergias para llevar a cabo acciones de control entre otras cosas

pero en este caso lo fundamental es reparar a las personas afectadas porque eso es a día de hoy lo que más urgencia tiene

que se haga en este momento el cómo no es tan importante como el qué pero parece que hoy gracias al pnv y al

es bien distinto ustedes se limitan a remitir al gobierno de españa lo aprobado en la ponencia y le instan a la elaboración de un proyecto de ley que tenga por objeto

reclamábamos en esa ponencia y que también se ha aprobado aquí por unanimidad por lo tanto ustedes hoy vienen a aprobar algo que ya hemos aprobado en esta cámara por unanimidad insisto a dilatar más esta cuestión en el tiempo

y desgraciadamente seguirá generando en los próximos años situaciones injustas afectados víctimas inocentes no entiendo señora lópez de ocariz a qué tipo de reserva suya o de su partido responde esta iniciativa que ha interpuesto y más cuando

cuando he visto su implicación en esta ponencia por cierto a mí también me parece usted una fantástica parlamentaria lo que sí tengo meridianamente

consigue de entrada dos efectos desenfoca los trabajos y las conclusiones de la ponencia y obstaculiza a mi juicio ese camino que marca la ponencia

y con mayores dificultades sencillamente no lo entiendo ese informe el de la ponencia nos detalla un cambio en la realidad y sin duda un cambio en la realidad en un periodo de tiempo muy corto de producto muy largo utilizado masivamente a producto extremadamente tóxico

un cambio en la realidad un drástico cambio en las necesidades de los afectados sus familias las personas

toda la sociedad en definitiva que necesita de respuesta desde las instituciones la prohibición en la producción comercialización y utilización

así como el seguimiento y la atención sanitaria de los afectados y la investigación de esta enfermedad en nuestro caso y en nuestra comunidad a través fundamentalmente de la dedicación de los y las profesionales de osalan y osakidetza en coordinación

la realización de estudios epidemiológicos todas estas aun siendo medidas esencialmente necesarias y a valorar muy positivamente tengamos en cuenta que aún hay países comocuba china rusia brasil y muchos otros donde no está prohibida y se sigue fabricando

decía que aun siendo medidas necesarias y positivas no son suficientes para una sociedad que quiera considerarse solidaria y avanzada en este escenario nació esta ponencia en la pasada legislatura teniendo como objeto analizar la posible creación de un fondo de compensación para los afectados por exposición al amianto

y los beneficios de su creación después del análisis

ya tenemos el dictamen que efectivamente como aquí se ha dicho aprobamos por unanimidad una respuesta unánime desde este parlamento ante la insuficiente respuesta

una respuesta unánime desde este parlamento a una nueva realidad donde hay que reconocer valorar y agradecer las aportaciones de los comparecientes comparecientes que han

la visión de los afectados y de sus familias la visión de los sindicatos de las empresas de los profesionales sanitarios de los investigadores de los profesionales jurídicos y de la administración también todo ello unido a un trabajo continuado y coordinado de los grupos parlamentarios a lo largo de estas dos legislaturas que de forma pionera en el estado han decidido afrontar uno de los temas más graves a los que se enfrentan miles de trabajadores familiares de trabajadores y ciudadanos

lo creo sinceramente personas que consideran necesaria la creación de un fondo de compensación que sirva para resarcir a los afectados en parte

el daño sufrido por la exposición en el pasado al amianto desde nuestro grupo parlamentario seguimos considerando esta cuestión un tema de justicia hacia las víctimas es por todo ello por lo que seguimos proponiendo a través de este acuerdo a las instituciones competentes del estado la creación de este fondo

nuestro acuerdo ha venido dado por coincidencia de planteamientos

señora lópez de ocariz agradecer al señor itxaso

de este acuerdo sin más y con el recuerdo hacia las víctimas eskerrik asko

me decía que la enmienda que ustedes han acordado dice que se va a enviar el informe

en este pleno al gobierno de españa y que además

que elabore un proyecto de ley para la creación del fondo yo sinceramente

creía que este informe de ponencia se había mandado al congreso porque así se acordó

pero ocho meses después nos encontramos que no hemos mandado el informe al congreso ocho meses después

que aún no tenemos el texto traducido de la ley francesa que va a ser el modelo para elaborar

y me dicen que ustedes tienen centrado todo el interés en la creación del fondo cuanto antes

ocho meses pero bueno cada uno tiene sus tiempos verdad y el señor aiartza

no es o el fondo o un plan de acción son dos cosas complementarias porque mire yo tengo el documento que en su día nos presentó la asociación de afectados por el amianto y decía

medidas para mejorar punto a

una relación de cosas a mejorar a la consejería de vivienda y también para ayuntamientos otra serie de cosas para hacer a la consejería de medio ambiente otra serie de cosas para hacer y luego decía al parlamento vasco sí y en el parlamento vasco decía

ver cuál es la posibilidad o los medios para crear el fondo de compensación pero es que son cosas complementarias no son o una cosa o la otra

creo que es bastante sencillo y claro que hay cosas para mejorar señor aiartza yo sé que usted no lo va a reconocer porque no reconoce nunca no le he visto hacer una

a la acción del gobierno y flaco favor le hace al gobierno

y usted flaco favor le hace con eso por lo tanto creo que en el tema de investigación tenemos un proyecto financiado por osalan parado tenemos edificios

tomase la iniciativa porque los ayuntamientos sí que lo hacen pero no en el gobierno vasco no saben nadie responde cómo actuar para analizar ese edificio y qué es lo que contiene y que no sabemos las consecuencias que está teniendo en el entorno

situaciones de ese tipo y eso si vas a medio ambiente

habrá que tomar alguna determinación ante determinadas necesidades y no son una o dos muchos puntos por lo tanto cuando hablamos del protocolo de rehabilitación es una cosa y la atención a edificios que están en desuso pues también es otro tema que ahí no toca absolutamente nadie ahí está parado

las consecuencias si no se sabe antes que está pasando y también hay una contaminación medioambiental y con esos afectados qué pasa o posibles afectados por lo tanto

me parece que es una exageración porque no somos perfectos y aunque sea el gobierno del pnv pero tampoco es perfecto

un estatus especial al ser nacionalista pero cometen los mismos errores

y que otros partidos son humanos menos mal son humanos y cometen errores hay que decirle al gobierno que a veces tiene que empeñarse más en determinadas actuaciones

y creo que este no es un tema baladí porque está en juego

la vida la vida de algunas personas que van creciendo en número

si ve en el diario de sesiones la comparecencia de los afectados que tuvo lugar ellos reconocen que aquí estamos más avanzados que en otras zonas de españa

sí que nos da al menos una cierta

que todo lo que usted dice es verdad en cuanto que siempre se puede mejorar en esos aspectos naturalmente que sí ha hablado del protocolo de rehabilitación pero sabe que esos protocolos están además asociados a normativa muy

produzcan en obras la presencia de amianto y el no cumplir con la normativa de aplicación obviamente

a los autores fuera de la norma de eso no se puede culpar a las instituciones señora blanco

porque las fuentes de financiación de un fondo de esa naturaleza tienen que estar digamos hechas precisamente allí donde surge digamos la responsabilidad

no fue un gobierno autonómico fue un gobierno de la nación quién tiene competencia exclusiva sobre la legislación laboral y por lo tanto también sobre la prevención el estado por lo tanto ahí hay una responsabilidad quién tiene responsabilidad sobre las enfermedades profesionales las mutuas y por lo tanto

sino que se trata de situar en el lugar que corresponden ciertas cosas y esta una de ellas un fondo de esta naturaleza suele tener un carácter estatal allí donde se ha

esa es digamos la razón de nuestro planteamiento

que se puedan hacer otras medidas medidas que lógicamente irán mejorando pues en fin con el paso del tiempo o por el control que haga este parlamento al ejecutivo

porque efectivamente hay casuística que podría dar lugar para hablar mucho pero cuando yo en

cuál es la idea nuestra por lo menos es que efectivamente el tema del amianto da de sí

no la sujetamos a plazo alguno porque ya vimos que en la legislatura anterior se acabó sin haber podido concretar porque es que esto da mucho de sí pero da tanto de sí que nos podríamos efectivamente perder en todo un debate amplísimo

por otra parte y desatender lo que es la pretensión fundamental de los afectados

creemos que esta cámara conforme a lo que he dicho también en un primer momento de que somos una comunidad que llevamos

debiera prestigiar sus tareas precisamente llevando esa iniciativa al lugar que corresponde eso es lo que nos ha animado y no otra cosa eskerrik asko itxaso jauna

ezetz esan duzue niegan la mala gestión de la subvención destinada por el gobierno vasco al proyecto de investigación de lo onkologiko ya veremos en qué queda eso se comprometen con los enfermos y enfermas y con la asociación a cuestiones que luego no materializan no llevan a cabo y rechazan a enmiendas a los presupuestos que presentamos otros grupos

pretendíamos de alguna manera mejorar la situación mientras ese fondo de compensación se consiga si algún día se consigue de manera transitoria decíamos mejorar esa

votan en contra eso sí se ponen de acuerdo para subvencionar equipos de petanca de fútbol o de ajedrez por eso les pregunto si para ustedes

de segunda con la enmienda que han firmado claro que estamos de acuerdo señor itxaso si

vamos a ver pero no quedamos en esa ponencia y en aquella comisión

mediante un proyecto de ley una propuesta de ley de transportes entonces para qué le instan al gobierno de madrid a hacer nada

y después acuerdan remitir al congreso de los diputados el acuerdo de esta ponencia pero es que no está remitido ya es que han pasado ocho meses y qué consiguen con eso

por lo menos por eso decíamos que esono quita para que mientras tanto aquí bajo nuestras competencias y bajo nuestra responsabilidad también

creemos que merecen algo más que atenderles correctamente cada vez que vienena este parlamento

no hacemos merecen algo más que trasladarles nuestra comprensión nuestro cariño nuestra solidaridad merecen que ya que somos sus representantes políticos

además de poner deberes al gobierno del estado español ese que repito de momento no hay y desde luego lo que no merecen

eskerrik asko berriro señora lópez de ocariz la iniciativa es suya

léase su justificación nos habla de la ponencia sí o no nos habla de la ponencia nos habla de la ponencia sí

en su iniciativa se habla de la ponencia y nosotros planteamos nuestras enmiendas en función de la iniciativa que usted plantea

unas fechas de referencia ya que hablamos de competencias y esas cuestiones unas fechas de referencia a nuestro entorno cercano

prohibición del amianto en el estado francés en los países del norte de europa fue bastante anterior pero algo de nuestro entorno

del amianto en el estado francés la comunidad autónoma de euskadi no puede prohibir el amianto el uso del amianto no tenemos esa competencia tampoco tenemos en mil novecientos noventa y seis y hoy competencias que deberíamos de tener conforme a nuestro estatuto son relaciones que antes me comentaba mil novecientos noventa y seis

por qué no hay prohibición mil novecientos noventa y seis por qué no hay prohibición

prohibición del amianto en el estado seis años después

seis años de retraso cuántos afectados más en seis años cuántos infectados más en seis años

los afectados franceses en dos mil dos dejan de sufrir su peregrinar por los juzgados pregunte usted a los afectados aquí

dos mil dieciséis aún no hay fondo de compensación en el estado catorce años de retraso catorce

como les gusta decir y usted intenta seguir acumulando retrasos no lo entiendo eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna

gracias el primer punto y los otros dos por favor si es posible